en esta propuesta sino únicamente a dos de ellas en concreto a la señora cristina ruiz

yo no daría el voto por asentimiento al menos por mi parte

el objetivo de la moción que hoy presentamos como consecuencia de la interpelación formulada al consejero de empleo y asuntos sociales es volver a reivindicar el acuerdo

que presentó a través de una iniciativa el grupo popular el grupo parlamentario popular con el objeto de elaborar un plan especial para las zonas

de álava los antecedentes de la presentación de esta moción cuyo debate estamos teniendo hoy en esta cámara son los siguientes se aprueba

del que álava se ha quedado fuera del que álava se ha quedado fuera

subvenciones a empresas que realicen inversión productiva generadora de empleo para impulsar zonas de la margen izquierda ría nervión y oiartzunaldea este programa indartu fue aprobado al amparo de la orden del

y este programa se encuadra dentro de un mapa de ayudas regionales aprobados por la comisión europea

para la concesión de incentivos regionales para la promoción de inversiones empresariales por lo tanto se puede decir que el objetivo de este plan

de empleo estamos hablando de una dotación de ocho millónes de euros que son subvenciones no reintegrables y que pueden suponer el diez por ciento de la inversión el conocimiento de este hecho motivó por parte de este grupo la presentación de esta proposición no de ley

de la generación del empleo en las zonas desfavorecidas de álava dicha iniciativa en ese momento

por unanimidad posteriormente sigo con los antecedentes conocimos que en la tramitación presupuestaria se incorporaron quinientos mil euros

y asuntos sociales a través de lanbide se incorporaban

que en forma de una subvención nominativa de una transferencia a la diputación foral de álava esa cantidad iba a ser

de acciones para el fomento del empleo sí que es cierto que en una respuesta a una pregunta formulada por este grupo por escrito se nos había dicho que esta transferencia todavía

materializado las acciones correspondientes al amparo de dicha subvención le preguntamos al consejero

el plan de empleo acordado por esta cámara especial para álava en esta cámara por unanimidad y

euros y que con esto se estaba dando cumplimiento al mandato de la cámara para nosotros desde luego es una cantidad insuficiente y sobre todo teniendo en cuenta

en los presupuestos y así lo defendimos por un importe de tres millónes de euros dirigida a un plan especial de empleo para las zonas desfavorecidas de álava y no solo tres millónes de euros este año sino hablábamos de un crédito de compromiso con tres millónes de euros para los presupuestos del año

es absolutamente insuficiente sobre todo teniendo en cuenta varias circunstancias teniendo en cuenta

de desempleo de algunas de las zonas existentes en álava como son oyón llodio agurain amurrio estábamos

estamos hablando de llodio con un diecinueve coma uno por ciento

esas cifras desde luego son bastante elevadas y exigen actuaciones

lo hemos defendido a lo largo del debate de las iniciativas

con el consejero pero a este dato de estas cifras de desempleo a mí sí me gustaría hoy sumar y sobre todo porque creo que hace el conocimiento de este hecho de esta mala noticia que es el anuncio de un ere por parte de tubos reunidos que va a tener una influencia muy clara

de ayala por lo tanto creo que el debate hoy de esta moción en ese sentido pues es muy oportuna

necesaria por lo tanto hoy presentamos la iniciativa para que se dé cumplimiento al acuerdo del doce de noviembre y queremos que ya de una vez por todas se subsane la discriminación que existe con el territorio histórico de álava el territorio histórico de álava por dos veces consecutivas se va a quedar fuera del

es decir las empresas que están radicadas en territorio alavés están sufriendo un claro agravio comparativo en relación a las empresas que están radicas en bizkaia y gipuzkoa en lo que respecta a

programa teniendo en cuenta que a bizkaia y gipuzkoa en virtud de este programa van a llegar dieciséis millónes de euros porque son dos veces dos años y en álava si tenemos en cuenta esta partida con la que parece que se conforma este gobierno

euros desde luego y teniendo en cuenta ya la enmienda que nosotros presentamos pues es una cantidad absolutamente insuficiente

interpelación que presentamos en el último pleno de control

dar cumplimiento al acuerdo porque nosotros entendemos que no se estaba dando cumplimiento a dicho acuerdo aprobado por unanimidad también por el grupo que sustenta

teníamos una forma muy distinta de entender cómo se cumplen los acuerdos y se estaba cumpliendo en cualquier caso de forma absolutamente raquítica con esos quinientos mil euros frente a los dieciséis millónes

pero nosotros viendo esa respuesta y viendo que es necesario subsanar a día de hoy dicho agravio comparativo que no está corregido es cuando hemos presentado otra vez de nuevo la moción

desde luego desde el grupo popular no podemos quedarnos satisfechos porque queremos que el gobierno vasco el departamento que usted preside señor consejero tiene mecanismos desde luego para poner en marcha para arbitrar los mecanismos necesarios para paliar estas situaciones de dificultad que están viviendo concretamente municipios de álava con las tasas de desempleo

a empresas radicadas en el territorio histórico de álava en el momento de la incipiente recuperación

creemos que no se puede mirar para otro lado creemos que es el momento de consolidar la recuperación económica y que desde luego es el momento de fomentar la competitividad

un acuerdo sobre todo viendo que se habían presentado enmiendas por tres grupos por parte de eh bildu no se ha presentado enmienda por lo tanto entendemos que

como el portavoz tendrá ocasión de explicar aquí el texto de la moción que pide el cumplimiento de un acuerdo de esta cámara el partido nacionalista vasco pues en su línea habitual cuando se le piden deberes al gobierno

los mandatos de la cámara que se siga cumpliendo sí hemos intentado con el partido nacionalista vasco llegar a una aproximación pero en el sentido de poner más deberes al gobierno y desde luego

insuficiente pero nos ha anunciado que previsiblemente lo sostendrá aquí su portavoz

que retira la enmienda porque va a apoyar la enmienda del partido socialista

por la actitud del partido socialista plasmada en el texto que ha planteado en este parlamento

a raíz de esta iniciativa que apoyó en el mes de noviembre cuando apoyó que se elaborara por parte del gobierno vasco un plan especial de empleo para álava

sorprendentemente digo porque además teniendo en cuenta que estamos en una cámara autonómica digo que el partido socialista insta a la diputación foral de álava a dar cumplimiento de esos

la verdad me he quedado absolutamente perpleja en primer lugar

en segundo lugar solo falta que le tengan que instar a la diputación foral de álava que creo que además

afirmo que en esa cámara se ha aprobado también esta iniciativa reclamando un plan especial de empleo para álava y que

con que la diputación foral de álava ponga en marcha

que según usted en la respuesta que nos proporcionó todavía no estaba o no tenía noticias de la ejecución no sé si tendrán a día de hoy

está el gobierno vasco que es el gobierno que tiene competencias en materia de empleo que tiene lanbide la transferencia en materia de políticas activas de empleo que además

cuando también había una enmienda del partido popular como digo por un importe de tres millónes de euros con un crédito

en el departamento de empleo y asuntos sociales por lo tanto me parece que la actitud

que hoy va a defender aquí el partido socialista habla por sí misma creo que

gobernando con el partido nacionalista vasco el partido nacionalista vasco que esté gobernando con el partido socialista en la diputación foral de álava pues flaco favor

cuando vemos que simplemente ambos partidos se conforman en la cámara en la que tenemos que instar al gobierno vasco al cumplimiento de los acuerdos al desarrollo a ampliar los acuerdos ya puestos en marcha y cuando se ven claramente que son insuficientes

con instar a la diputación foral de álava que como digo faltaría más a que de ejecución o ponga en marcha o materialice como queramos llamarlo esa

nosotros hemos firmado una enmienda de transacción ya digo después de intentar alguna aproximación pero obviamente

que insta solo a la diputación foral de álava a dar cumplimiento a algo que se supone que va de suyo ya sería el colmo que sean incapaces de desaprovechar

que llegan a álava y que para nosotros son absolutamente insuficientes por eso hemos firmado una enmienda de transacción

enmendante que obviamente se aproximada a lo propuesto por el partido popular a que se dé cumplimiento al acuerdo de doce de noviembre de dos mil cinco relativo a la elaboración de un plan especial de empleo para álava y como en relación a los acuerdos parlamentarios este gobierno suele tener

pues hemos incluido un nuevo párrafo que venía en una

que se comparezca en la comisión correspondiente en el plazo de dos meses desde la aprobación de esta iniciativa para dar cuenta de los resultados de si se va a cumplir no se va a cumplir el citado plan por lo tanto este es el acuerdo creo que es el acuerdo

la actitud del partido nacionalista vasco y el partido socialista que van a ir de la mano en la enmienda

del acuerdo anteriormente suscrito y desde luego que no va nada en consecuencia en la defensa de los intereses de álava por lo tanto los alaveses yo creo que tienen hoy que ser muy conscientes de que el

cogobernando con el partido nacionalista en la diputación sirve para neutralizar al partido socialista en el parlamento vasco porque luego

muchas gracias presidenta buenos días señorías

bueno no quiero empezar la intervención de nuestro grupo en el día de hoy sin hacer un

de sestao de zumárraga y todas aquellas empresas auxiliares que en estos momentos se encuentran en una situación difícil

bien respecto a lo que nos trae en este punto señora garrido

a la vista de su iniciativa en un primer momento pues me resultó relativamente fácil acoger el texto porque bueno solicitar el cumplimiento de un acuerdo que se ha adoptado en esta cámara pues no parece que tenga

dificultad es decir ratificarse en lo que ya se ha dicho pero claro la política es una actividad sinuosa muchas veces y hay que tratar de localizar

de aquellos que traen iniciativas aparentemente fáciles y sencillas de suscribir

la que nos trae porque usted señora garrido apela al acuerdo del doce de noviembre en el que efectivamente se planteaba la necesidad de llevar a cabo una serie de planes de empleo en las áreas desfavorecidas de álava y sus comarcas más perjudicadas

ese acuerdo esa propuesta que se adoptó en

ya se está ejecutando ya se está realizando y esa es la razón por la que nuestra enmienda lo que plantea es que toda esa planificación todo ese trabajo que se ha venido desarrollando

o ya a punto de concluir lo que quedaría pendiente es su ejecución por eso planteamos que se ejecute en los próximos seis meses ustedes nos traen una propuesta

medio millón de euros como todo esto es conocido por ustedes nos parecía que la mera ratificación se quedaba corta y los socialistas siempre tenemos pretensiones un poco más ambiciosas que conformarnos con el statu quo y en este caso

porque lo que queremos pensar es que la intención del proponente no es quedarse diciendo lo que decíamos hace medio año queremos pensar que pasados seis meses se trata de trasladar el mandato parlamentario a acciones concretas y en eso estamos

durante otros cuatro años en la que la diputación de álava estaba dirigida por ustedes señora garrido y este es el objetivo de nuestra propuesta

pero no hoy sino desde que se tomó posesión en la actual diputación de que nuestra diputada de fomento y de empleo la señora cristina gonzález asumió la cartera y que en diálogo permanente con los municipios

lleva adelante los distintos planes con los que se está trabajando y de ello se dará cumplida cuenta en fin en horas o en los próximos días y se está trabajando en las zonas desfavorecidas de álava que eran zonas desfavorecidas también cuando ustedes gobernaban es decir los indicadores macroeconómicos a los que usted hace referencia no son de hoy son vienen de tiempo atrás

esta coordinación comenzó en septiembre para aprovechar al máximo los recursos dedicados al empleo de todas las administraciones públicas y en la negociación presupuestaria

resulta que estábamos haciendo partidas que beneficiaban a los ciudadanos a los de oyón a los de amurrio a los de llodio áreas verdaderamente castigadas por un alto desempleo

como he venido diciendo anteriormente así que los planes de formación que ya se realizaban además del programa de planes locales de empleo que llevan su curso por cierto también a iniciativa socialista en esta cámara se suma ahora estos nuevos programas en elaboración decimos nuevos porque hasta la diputación foral de álava tenía dos convocatorias de empleo una de quinientos mil euros de formación que además no estaba orientada a la empleabilidad

convocatorias que no se habían modificado en toda la legislatura anterior a pesar de la necesidad de hacer todos los esfuerzos necesarios para que el dinero dedicado a formación sirviera realmente para la empleabilidad

la diputación foral de álava bajo el mandato del pp no buscó financiación en otras instituciones como la unión europea y fue cambiar de signo el gobierno

de empleo joven para presentarlas a la convocatoria de empleo joven de la unión europea

es la primera vez que la diputación alavesa presenta un proyecto en un foro donde se reservan fondos a quienes lo reclaman para fomentar el empleo no había más que presentarse

entendíamos que su propuesta pues trata de buscar un protagonismo por parte de su grupo que no lo ejerció cuando tenían responsabilidades políticas y efectivamente

euros no serán suficientes para atender todas las necesidades de las zonas desfavorecidas de álava pero sin duda

proposiciones no de ley que no nos llevan a ninguna parte lo que hace falta son acuerdos lo que hace falta es efectivamente lograr dentro de lo que es

conseguir los acuerdos necesarios para impulsar aquellas acciones que se ven necesarias que no serán suficientes que será menester en fin dotar con más fondos y seguir en el empeño sin cejar en él por supuesto que sí

esto es ya algo y como le digo la diputación de álava a la que le instamos es porque efectivamente es la que en colaboración con lanbide ha puesto en marcha la planificación de esos programas de esos planes de empleo que

de tal manera que ahora solo sería necesario obtener

un plazo de seis meses para que en ese tiempo se lleven a cabo dichos planes creo haber explicado que las razones no son que estemos en contra de subvencionar o financiar las áreas desfavorecidas

que cuando se tienen responsabilidades de gobierno no se lleva a cabo todas estas actividades y todos estos compromisos y estos esfuerzos presupuestarios que ustedes reclaman pero cuando se está en la oposición entonces sí eso

y esa es la razón por la que no hemos buscado el acuerdo con usted en el día de hoy señora garrido nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna

sí muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos señora consejera señor consejero a nosotros en principio nos parecía bien la iniciativa planteada

y que planteaba algo tan sencillo como que el gobierno cumpla un mandato parlamentario aprobado por unanimidad no hace demasiado tiempo por esta cámara lo que hicimos nosotros a través de nuestra enmienda de adición fue tratar de

esta iniciativa original planteada por el grupo popular a la vista también de las explicaciones dadas por el consejero durante el pleno último

y por lo tanto lo que hicimos fue proponer una enmienda de adición para instar al gobierno vasco a comparecer en la comisión correspondiente en el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta iniciativa para explicar los resultados obtenidos de el cumplimiento y aplicación del acuerdo aprobado el doce de noviembre

relativa a la elaboración de un plan especial de empleo para las zonas desfavorecidas de álava

añadíamos y esto es así porque el consejero en aquel pleno de control insistía en que efectivamente ese acuerdo plenario había sido cumplido por parte

lo mínimo que tiene que hacer es presentar los resultados

en la comisión correspondiente y nosotros pensamos efectivamente que ese acuerdo no se ha cumplido pero el consejero insistía en que ese acuerdo ya ha sido cumplido bien pues vayamos a

cuáles han sido los resultados obtenidos de esas acciones impulsadas por este gobierno si efectivamente esas zonas desfavorecidas que a todos nos preocupa

o siguen básicamente como estaban hace algunos meses y mirar también al futuro efectivamente qué es lo que se puede hacer de cara al futuro para que esas zonas desfavorecidas se encuentren en mejor situación en los próximos meses porque tal y como se ha señalado lo cierto es que estas zonas desfavorecidas son zonas desfavorecidas desde hace demasiado tiempo y por lo tanto la responsabilidad de ello no es solamente de este gobierno

y de quienes han gobernado incluso también españa y quienes han gobernado la propia diputación foral de álava por lo tanto la responsabilidad lógicamente es

mantenido o soportado esos diferentes gobiernos ciertamente hemos llegado a un acuerdo transaccional que lo que hace es un sumatorio entre la iniciativa original y la enmienda de adición del grupo upyd

no me siento cómodo con determinados victimistas que habitualmente se realizan en esta cámara en relación a determinados territorios históricos de nuestra comunidad autónoma me parece que esto no es bueno

enfrentar los agravios comparativos no es bueno dar más importancia a esas supuestas diferencias entre unos territorios y otros que a la propia situación en la que se encuentran determinados municipios de euskadi

o de gipuzkoa creo que esto no es bueno no me gusta no me siento cómodo cuando alguien trae una iniciativa

intervención pues concluimos que tiene más interés en tratar de articular un discurso digamos electoralista

social que trate de resolver los problemas reales de la ciudadanía y ciertamente observando la intervención de la señora laura garrido

la insistencia por parte de esta parlamentaria en llamar la atención sobre la discriminación que sufre álava creo que esto no es bueno en varias ocasiones lo señala la señora garrido dice en aquella interpelación que álava ha sido discriminada respecto

dice que se trata de subsanar el agravio comparativo que hay con el territorio histórico de álava en varias ocasiones apunta que lo que llega

añade que existe por lo tanto un agravio comparativo que no está siendo subsanado

con el territorio histórico de álava este discurso a mí no me gusta no me parece que sea positivo y no me parece que aporte nada de tal forma

inicialmente se suponía que era social de preocupación por determinadas zonas desfavorecidas de preocupación por la situación en la que se encuentran miles de ciudadanos en este caso alaveses

en otra cosa se convierte en una iniciativa que parece ser más electoralista más de agravio comparativo entre territorios más con el propósito de enfrentar a

que a buscar la solución de unos determinados problemas qué es lo importante en este caso

llodio o agurain que tienen

prácticamente del veinticinco por ciento esto es lo que hay que subsanar por lo tanto

hay que hablar más de medidas concretas para subsanar estos problemas resolver estos problemas de estos ciudadanos que viven en esas localidades que

territoriales no me gusta a mí que se trate de fomentar enfrentamientos entre territorios históricos no me parece que sea nada bueno

nos parece razonable se trata de que el gobierno cumpla ese acuerdo parlamentario se trata de

se trata de que si efectivamente ese acuerdo parlamentario se ha cumplido el consejero correspondiente pase por la comisión y explique no solamente lo que se ha hecho sino sobre todo cuáles han sido los resultados obtenidos en fin en conclusión y en definitiva atendamos a los ciudadanos con menos recursos

en peor situación económica y con mayores niveles de paro no enfrentemos a unos territorios con otros no interesa a nadie no es bueno para nadie y creo que perjudica al conjunto de euskadi nada más y gracias

el debate de noviembre se dio en los términos apropiados se consiguió un acuerdo amplio sobre

se concretaba la necesidad de que el gobierno se implicase ante la grave situación en la que se encontraba araba evidentemente no era la panacea pero por lo menos marcó una dirección

las demandas que se realizaban anteriormente quita la responsabilidad a este gobierno y sitúa el foco en las juntas generales de araba en los ayuntamientos y en lanbide

si bien y esto creo que nadie aquí puede negar limitar el problema a un problema de empleo no solo es hacer trampas sino es engañarnos a los alaveses

es un problema de desindustrialización evidente es un problema de falta de proyectos industriales que renovasen

es una falta evidente de implicación institucional durante décadas

depauperando las condiciones laborales los salarios y la calidad de los empleos mientras ofrecían ayudas públicas a las empresas

deslocalizado sus empresas o pretenden hacerlo araba es un herrialde diferenciado del resto la realidad demográfica hace que sea

aquí en gasteiz se concentra un porcentaje altísimo de la población

el resto de araba salvo en casos muy concretos se compone de pequeños núcleos rurales que históricamente han venido desarrollando su actividad económica dentro del sector primario

grado de industrialización cuál ha sido el problema de araba durante décadas pues bien sencillo mientras el modelo industrial iba quedándose y muy concentrado en pocas empresas la administración pública en manos de pp y pnv se dedicaba a financiar y apoyar a un sector muy concreto y deficitario la logística

araba en pocas décadas pasó a contar con multitud de centros logísticos

que el desarrollo local y de las cuadrillas solo vendría a través de estos centros los cuales generarían multitud de empleo pero como suele suceder en la política alavesa fue todo una gran mentira al igual el plan de maroto en betoño lo fue epsilon lo fue hiriko lo será la universidad elitista que se plantea para gasteiz y lo son todos los proyectos que solo pretenden favorecer a unos pocos utilizando el dinero público la realidad en el caso de los centros industriales

de los centros que se construyeron ayudaron a la perpetración

en otros casos ayudaron a que algunos ayuntamientos pudiesen hipotecarse hasta el extremo gracias a la venta de suelo otro pelotazo que ahora están pagando los y las vecinas y por otro lado ese modelo ayudó a cuatro constructoras a seguir haciendo muchísimo dinero

mientras que por un lado empresas industriales eran absorbidas por multinacionales y perdíamos el control local sobre las mismas la administración potenciaba la construcción de centros logísticos e industriales pero sin industrias así y como ejemplo podemos decir que en menos de cien kilómetros tenemos el parque de asparrena agurain

entre otros la mayoría medio vacios a día de hoy o vacios del todo

sino que depauperó el existente pero con ella algunos hicieron muchísimo dinero batzuei balio izan zitzaien poltsikoak diruz betetzeko da zuen guztien porrot politikoa y ese es su fracaso político el de todos ustedes por otro lado nos hablan de los planes de empleo para no cubrir empleo alguno el problema se encuentra en la curva de la oferta pero en ese sentido este gobierno está perdido no sabe los sectores en los que debe invertir ni absolutamente nada formación como solución gente formada sin posibilidad de encontrar un empleo porque no

pues evidentemente al desarrollo local a zonas como aiaraldea que están siendo desindustrializadas por las deslocalizaciones ejemplo tubos reunidos

un empleo para los y las vecinas zonas como rioja alavesa en las que la especialización y dependencia del sector vinícola o derivados es altísima por la falta de alternativas laborales todo ello qué provoca pues el deterioro aún mayor de las condiciones laborales mayores tasas de desempleo

y sentimiento de desprotección de la ciudadanía por la inacción de la administración pública esas son las consecuencias de unas muy malas políticas industriales en nuestro herrialde la falta de un plan industrial estratégico por parte del gobierno de gasteiz

los alaveses por encima de los intereses de las constructoras o las multinacionales de turno y lo más peligroso de todo la dependencia total para el empleo

nos han abocado a un abismo total con sus políticas del pasado y hoy en vez de dar seguridad de mantener lo aprobado aquí en este parlamento nos vuelven a cambiar el terreno de juego lo cual genera incertidumbre falta de esperanza en el futuro y sobre todo

absoluta del tiempo deberíamos estar buscando soluciones y no aprobando palabras vacías que no solucionan ni dicen absolutamente nada

en primer lugar mostrar nuestra solidaridad con el sector del acero vasco que lo está pasando muy mal en mayor medida por el dumping del acero chino y por el precio de la energía azaroan

tokiko garapena eta gauza bera egiten dute el gobierno vasco y la diputación foral de álava

y de manera concreta con los ayuntamientos de las zonas desfavorecidas de álava como son oyón amurrio o llodio

trabajando en común aquí también con trabajo con paciencia y con tesón para contrarrestar

contra la reactivación económica de álava y su industria especialmente en estos cuatro últimos años cuando ha estado gobernando en españa con mayoría absoluta

solamente a través de lanbide en álava hay invertidos ya más de tres millónes y medio en planes de empleo y en planes locales vigentes hasta mayo de este año que aún están los del dos mil quince

para este programa especial para las zonas desfavorecidas de álava que el partido popular con mayoría absoluta en el gobierno de españa se encargó de que no estarían

por lo tanto pese al partido popular la recuperación del sector industrial de euskadi y en álava es un hecho

para crear actividad productiva en álava y en euskadi o el consorcio vasco de internacionalización

en todas sus fases a través de un nuevo modelo de gobernanza en el que siete instituciones trabajan en común el gobierno vasco las tres diputaciones y las tres cámaras de comercio

porque si hacemos un poco de memoria en álava desde finales del dos mil once coincidiendo con la mayoría absoluta del partido popular en el gobierno de españa

un ataque continuo con premeditación y alevosía esto se traduce en el área de logística de álava uno de nuestros puntos fuertes que pese a contar con un aeropuerto con la pista más larga y protegida del norte con tres mil seiscientos metros con los más avanzados elementos para operar en situaciones muy reducidas de visibilidad

recibiendo incluso en datos del dos mil nueve un vuelo desviado de otros aeropuertos cada dos días y convertido con su puesto de inspección fronterizo en uno de los aeropuertos de carga más importante del estado español

el aeropuerto de foronda se convierte de la noche a la mañana en objeto de acoso y derribo desde el dos mil doce por el partido popular gobernado en españa con mayoría

a través del ministerio de fomento se le reduce de veinticuatro horas a doce horas se le anula en europa el puesto de inspección fronterizo

y por lo tanto toda la carga que tenga que ver con animales y perecederos desaparece
se refuerza el aeropuerto de foronda el de zaragoza isiltasuna mesedez lópez de ocariz andrea ez da zure turnoa

andrea isiltasuna con base de mercancías de la zona norte de cuarenta y cinco mil toneladas estamos hablando de la actividad económica y el desarrollo alavés

de vez en cuando se ponen el disfraz y tenemos aquí unos minutos de apoyo alavés pero el resto de los otros trescientos sesenta y cuatro días es lo que no tienen y ahora tienen que escuchar se refuerza el aeropuerto de zaragoza como base de mercancías de la zona norte de cuarenta y cinco mil toneladas en dos mil doce

al aeropuerto de burgos y al de logroño se le duplican las horas de apertura y se le ceden

por lo tanto foronda a finales les dos mil doce ya había perdido tres

y si había que dejar las cosas más claras en dos mil trece para certificar con claridad su apuesta de acoso y derribo a álava y al aeropuerto de foronda

a los equipos de la acb de baloncesto aterrizar en foronda para la celebración de la copa del rey que se celebra en vitoria esta sí que es otra foto clarísima para el evento de la copa del rey en el dos mil trece de baloncesto

pues ya lo vemos manteniéndonos como el cuarto aeropuerto de carga del estado

sin la aduana de perecederos que es el punto de inspección fronterizo se acuerdan

en zaragoza y el noventa por ciento de toda la carga dependiendo de una única compañía

hasta una triste ampliación le cuesta más de un año el conseguirla por lo tanto eso sí promesas

popular cuando se cuelga el disfraz de veinticuatro horas eso esperó lo que nos cuesta es que este disfraz solo lo lleva veinticuatro horas como bien dice la foto

por parte del partido popular gobernando en españa con mayoría absoluta en el dos mil trece

de finalidad regional dos mil catorce dos mil veinte y cuáles son estas directrices estas reglas de medir

para que estas regiones puedan acceder a estas ayudas que suponen un diez por ciento más de inversión para que no sean consideradas ayudas de estado estas ayudas la regla de medir que ustedes eligen como gobierno del estado en esa reunión en el dos mil trece exige que

en unas zonas desfavorecidas cualquier alavés que se precie

no hay manera de entrar en esa regla no hay manera de entrar si está limitada por ese territorio histórico sin embargo si habrían permitido una continuidad con otro territorio histórico

en ese año dos mil trece ahora mismo todo el valle de ayala podía estar unido con basauri y tener una zona desfavorecida ahí y acceder a esas ayudas

se va a quedar todos los seis años que tiene en ese mapa de ayudas regionales

por lo tanto cuando al año siguiente en dos mil catorce se publica este mapa de ayudas regionales qué vamos a esperar

pero a que no saben quién es el que no se queda fuera de este mapa de ayudas regionales con esta escala con este mapa que el gobierno de españa liderado por el partido popular sabe quién es el que no se queda fuera toledo y castilla la mancha pregúntele a aernnova porqué se va a toledo pregúntele porqué crea allí ciento cuarenta y cinco

que aquí se los cepilla pues porque tiene

en dos mil trece y que en dos mil catorce cuando se aprueba ese mapa de ayudas regionales dos mil catorce dos mil veinte pues lógicamente álava no está

y el partido popular sigue con su disfraz de apoyo hoy tenemos unos minutos más de gloria con este para hacer ese sumatorio de veinticuatro horas que conseguirán a lo largo del dos mil dieciséis

seguiremos contrarrestando siempre con más trabajo trabajo y trabajo porque no hay otra manera de conseguirlo

gracias señora presidenta me voy a centrar en el señor itxaso y luego me detendré

que desear y parece mentira que sea un alavés y conocedor de la realidad alavesa y precisamente por esa condición de alavés pues yo creo que

sino en foronda también habrá que preguntarse por qué la situación de foronda llegó como llegó

desde la diputación foral alavesa y desde el gobierno vasco por foronda por qué foronda llegó a ser un aeropuerto a punto de cerrar y hubo que habilitar y poner en marcha un plan

la poca actividad que había para corregir el sobredimensionamiento

sí sí pero mientras tanto el gobierno vasco en todos los presupuestos todos los años cero para foronda por lo tanto no me venga aquí dando lecciones de foronda

algún durillo para el aeropuerto de foronda todos estos años en los presupuestos y no ha sido capaz de conseguir nada y a raíz de que el gobierno del partido popular

que sí sí ustedes gobernaron también con el gobierno zapatero cogobernaron con el gobierno zapatero por lo tanto tendrán alguna responsabilidad también en la situación

todos esos presupuestos que aumentaron el déficit que aumentaron el desempleo

de la mano del partido socialista como sostén de zapatero pero entonces de foronda no se debían de preocupar mucho eso sí luego cuando llegó patxi lópez y había mucha prisa

y retrasar la transferencia de las políticas activas de empleo esa es la agenda vasca y eso es mirar por los intereses de los vascos que suele hacer el pnv cuando llega

de la verdad por lo tanto de foronda las lecciones las justas porque a raíz del plan de eficiencia

mejorar las cifras de foronda especialmente de forma muy clara a raíz del año dos mil catorce por lo tanto

y sobre todo hagan una autocritica de la puesta que el partido nacionalista vasco ha hecho

porque ha estado muchos en el poder para haber puesto si quiera un durillo por el aeropuerto de foronda al partido

al señor carro desde luego usted señor itxaso ha tenido que hacer bastantes equilibrios hoy aquí en esta

yo tengo la intervención suya de aquí y decía claramente

un plan especial de empleo para álava usted se conforma con esa cantidad de quinientos mil euros desde luego nosotros no somos más ambiciosos y hace más ambiciosos que ustedes en el propio presupuesto

pudieran tener un dinero en estos presupuestos por un importe de tres millónes de euros con un crédito compromiso el año siguiente de otros tres millónes de euros para precisamente paliar la situación del desempleo de las zonas desfavorecidas de álava que como usted sabe tienen los índices de desempleo que tiene

que le cuenten de forma exhaustiva cuál es la situación de álava y desde luego era necesario un plan de estas características yo desde luego me parece que usted ha tenido que hacer hoy aquí una pirueta para justificar lo injustificable

desde luego que cogobierno el partido socialista con el partido nacionalista vasco en la diputación foral de álava porque se tiene que llegar a desdecir

en su momento suscribió que eran buenos para álava que era como la elaboración de ese plan especial de empleo para álava y fíjese además que usted me ha llegado a reconocer solo me voy a ceñir a las conversaciones a lo que ha dicho usted en esta tribuna porque ya sabe que no me gusta traer a colación conversaciones de pasillo

que estuvieron apunto de aprobar la iniciativa original claro en aras a la coherencia era lo que tenían que haber dicho pero tras la llamada de la diputación foral ustedes claudican

y por lo tanto pasan a ser el nuevo bastón del partido nacionalista vasco

a dado para el territorio histórico de álava nosotros seguimos entendiendo que hay una realidad que

en territorio alavés estamos hablando de dieciséis millónes

decía de forma muy claramente que álava había que subsanar y subsanar ese agravio comparativo

en esa enmienda absolutamente raquítica que consiguió el partido socialista absolutamente insuficiente besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea

su problemática y en este caso ocurre que yo no soy del territorio alavés pero usted debe de agradecerlo porque si hubiera sido seguramente habría tenido que hacer una intervención como ha hecho el señor lópez de munain o el señor carro quiero decir

que inicialmente a una lectura superficial de su iniciativa pues en fin por aquello de que la pereza casi siempre está por delante

vamos a ratificarlo pero he dicho no que cuando se hace una lectura un poco más digamos

ratifíquese en el acuerdo anterior bueno no era tan inocente efectivamente ustedes trataban en este momento y con este asunto bueno de aparecer como valedores de en fin la causa de álava de sus zonas desfavorecidas bien está bien pero

en fin a buenas horas mangas verdes porque todas esas ese rosario de calamidades que usted plantea

y cómo es posible que esto ocurra con un partido popular que ha gobernado con mayoría absoluta en españa y que tiene

no estamos exonerando al gobierno de ninguna responsabilidad los acuerdos que se han adoptado lo vinculan y justamente en la ejecución de esos planes la diputación de álava

con lanbide lanbide al fin y al cabo no deja de ser gobierno y entonces esos planes se han ejecutado en colaboración entre estos ámbitos institucionales lanbide

que pilota todo este asunto y nosotros rechazábamos la iniciativa señora garrido porque usted plantea que se lleve a cabo un plan especial en las zonas desfavorecidas y lo que le he venido a decir es no esos planes están están conclusos o apunto de concluir pero vamos que se van a presentar seguramente en fin en pocas fechas o seguidamente y que su presentación vendrá lógicamente la necesidad de transferencia de fondos para ejecutarlo y ahí es donde damos ese margen ese plazo de seis meses para hacerlo

en cuanto el acuerdo del doce de noviembre como todos los acuerdos de esta cámara sigue teniendo vigencia o sea

se establezca o lo que surja de aquí no conturba ni perturba otros acuerdos anteriores esos acuerdos a los que nosotros nos sumamos en su momento siguen

en principio hemos llegado a un acuerdo concreto no sé si esa es la intención o no es la intención pero en todo caso nosotros llegado el caso cuando tenemos que censurar y reprochar al gobierno lo hacemos lo hacemos sin ningún tipo

su iniciativa señora garrido nos ha parecido que tenía un componente de oportunismo de suficiente entidad como para

pararlo pararlo y hacer lógicamente la critica correspondiente

y veo que también euskal herria bildu

aun no coincidiendo seguramente en los planteamientos finales sí estamos más o menos compartiendo un diagnóstico sobre lo que ha sido el papel de su partido tanto en el gobierno de españa como en el gobierno de la diputación de álava donde los recursos empleados para estos menesteres eran claramente inferiores

decía anteriormente y yo creo qué es una de las claves más allá de por donde se quiere llevar este debate

del señor toña echo en falta la presencia de otra de las consejeras que en este caso sí sería importante ya que por lo menos desde euskal herria bildu entendemos que el empleo o la promoción del empleo tiene que ir ligada

bastante en falta la no presencia de la señora tapia

a este gobierno con toda mi intervención anterior es decir álava vive en una situación en la que la industria

por un lado por el cierre de muchas de dichas empresas cierre de pequeñas empresas también como podían ser talleres que se dedicaban a suministrar a estas grandes empresas y sobre todo porque existe una falta evidente de control sobre dichas empresas por una razón fundamental porque la mayoría son ya hoy multinacionales multinacionales que luego van a negociar con las instituciones y lo hacen de una manera muy clara que es o me das subvenciones o me largo del territorio araba tiene una dependencia total económicamente seguramente de la actividad

pero es que es más grave todavía gasteiz tiene una dependencia total

esas dos empresas cerrasen el tejido

al garete con lo cual araba entera se iría al garete con lo cual y por eso

en positivo no es una cuestión únicamente de empleo no se trata de invertir en formación se trata de crear empleo

en las juntas generales de araba es mediante una serie de partidas que hemos negociado directamente con ustedes con su partido y lo hemos negociado de la siguiente manera por un lado en la formación en las cuadrillas y en eso comparto con el señor itxaso que es importante e incluso depende del departamento de cristina gonzález

y otras dos partidas más importantes todavía que van a industria

para poner en marcha que las cuadrillas los ayuntamientos y las zonas que están más castigadas puedan reactivar

mientras tanto seguiremos como tristemente he visto que hace el señor carro poniendo en valor la logística

a una situación límite que es apostar únicamente por la logística pues seguimos con ello y cuando se habla de foronda evidentemente foronda es un valor a tener en cuenta

y qué sucedió allí porque claro las responsabilidades aquí para madrid todas y en eso también comparto con ustedes pero las responsabilidades de ustedes

sin su participación con lo cual vamos a ponernos todos y todas la responsabilidad que tenemos

que este gobierno también tiene una responsabilidad pero no solo con el empleo lo tiene con la reindustrialización y también la tiene con la reindustrialización de araba no podemos tener más pabellones industriales cerrados sin actividad alguna

la agencia de desarrollo de álava que se dedica a comprar y vender terreno

y eso es lo que está hoy negociando euskal herria bildu con ustedes en la diputación de álava de eso estamos hablando estamos haciendo una propuesta en positivo álava no se puede quedar no debe quedarse no solo podemos apostar por la formación debemos apostar por abrir industria y en eso este gobierno tiene mucho que decir porque o hace ya

en los que debemos avanzar como pueblo y debemos invertir como pueblo o nuestro futuro es muy

de muy pocas empresas y la mayoría de ellas multinacionales tanto el partido popular como el partido nacionalista vasco decían dos cosas que a mí me ha llamado mucho

para quienes para ustedes claro como siempre pero es que ustedes tampoco han notado la crisis

es evidente y cómo lo defendía usted basado en modelo de gobernanza qué quiere decir esto de qué nos está hablando cosas concretas necesitamos

y necesitamos sectores de actividad nuevos pero la responsabilidad es de este gobierno de la diputación de los ayuntamientos y de todas las instituciones de araba
asuman ustedes también la suya eskerrik asko lópez de munain jauna

legebiltzarburu andrea hemos retirado nuestra enmienda y votaremos a favor de la del partido socialista

es que es esa en los últimos cuatro años y que ha coincidido con que han estado gobernando con mayoría absoluta en el gobierno de españa

y hechos reales que lo que han demostrado es que es un ataque sistemático a la reactivación económica de álava y se han cargado el aeropuerto de foronda

con todo el mapa de ayudas regionales que nos hemos quedado los alaveses sin esa posibilidad de que ese diez por ciento de más de ayudas

desde el dos mil catorce hasta el dos mil veinte que vamos a estar los alaveses

resulta que eran ustedes los que aprobaron la regla que elegimos para medir esa regla

cualquier alavés sabe que no hay manera de encontrar dentro del territorio histórico cincuenta mil alaveses juntos con zonas desfavorecidas sin embargo a nada que habrían cambiado la regla de medir es probable que también habría entrado toledo como ya lo hemos comentado antes

y de esta manera sin embargo como eligieron en el dos mil trece ustedes desde el gobierno de españa con mayoría absoluta y aprobaron en europa

han elegido una escala y una regla de medir que lo que sí que entra es toledo y toledo fíjese que bien pregúntele a aernnova si no sabe si ha entrado toledo

que rápidamente se lleva allí una empresa a crear ciento cuarenta y cinco puestos y

por una regla de medir que ustedes eligieron desde el dos mil trece

y también le podía hablar del tema de la internalización claro que álava necesita

y también más internalización y ese consorcio con todas las administraciones juntas las tres diputaciones el gobierno vasco las tres cámaras de comercio así hay que trabajar

dispuestos a empujar pero como le decía en esas ayudas internacionales también ustedes querían la foto y la foto ya la tuvieron ustedes bien clara en septiembre para decirle a la empresa pionera en internalización aquí en álava

exactamente qué papeles tiene que presentar una empresa para vender una

y son ustedes mismos los que les dicen qué documentación tienen que llevar la que a continuación les coge con más de cien policías y les lleva allí como si fuesen terroristas por qué porque parece ser que esa máquina luego la venden a terceros países

la foto querían la foto como la foto de la acb

que en dos mil trece aterricen para jugar aquí la copa del rey de baloncesto y todo por qué porque tienen no sé tienen ese ataque sistemático

en el que se vuelven a colocar el disfraz de veinticuatro horas y seguro que con estos minutos irá sumando usted a lo largo del año esas veinticuatro horas y por fin tendrán esas veinticuatro horas pero es que quedan otros trescientos sesenta y cuatro días del año que los alaveses también queremos esos trescientos sesenta y cuatro días al año

es verdad que hay algunas de las cuestiones expresadas y que las oímos también hace quince días con la que no podemos dejar de estar de acuerdo es verdad que el paro y la situación laboral es la principal preocupación y no solo en toda españa sino también en euskadi porque

y también hemos sufrido en primera persona los efectos de la crisis y del desempleo y es verdad como se ha dicho aquí y lo ponía también en la iniciativa

los poderes públicos tenemos la obligación política pero sobre todo la obligación moral de articular los mecanismos necesarios para ofrecer una respuesta satisfactoria a esas necesidades que nos plantean los ciudadanos y no nos olvidemos y es verdad que la primera necesidad que todos plantean es la tener un empleo digno y estable cuando desde

pues lo que ponemos de manifiesto es el fracaso de nuestras de esas políticas dirigidas

pero nosotros también creemos que eso hay que hacerlo desde la responsabilidad y no desde la

para este grupo el empleo siempre ha sido una preocupación en esta cámara y así interpelamos al señor aburto con relación al empleo ya a finales del año dos mil trece

se había vendido mucho humo pero los resultados no se veían se habían hecho muchas promesas en campaña electoral

no llegaban en la moción consecuencia de aquella interpelación solicité que la ley de empleo que según el calendario legislativo tenía prevista su presentación en el primer semestre del año dos mil quince

finalmente llegamos a una transacción para que fuera una prioridad en los trabajos legislativos pero parece que esa prioridad no lo ha sido porque estamos finalizando el primer trimestre del dos mil dieciséis y aquí seguimos sin ley de empleo

dejando atrás una pésima gestión como se demuestra en la organización de lanbide y como se demuestra de los datos de empleo que ha habido

y consideramos y se fue también como digo sin aprobar sin presentar la ley de empleo y consideramos que esta ley más allá de servir al enfrentamiento toña versus aburto puede

para que el ejecutivo y este parlamento puedan detallar las acciones que impulsen un mercado laboral más justo desde una óptica de la competitividad y la sostenibilidad

y los hechos la verdad es que hablan por sí solo yo dije en aquel momento y lo vuelvo a repetir ahora

empezaba a desmoronarse y a desmontarse y los datos de empleo de esta legislatura y la actuación de este gobierno en esta legislatura así lo pone de manifiesto

el consejero cuando contesto aquí a la interpelación que ha dado origen a esta iniciativa puso de manifiesto una actitud que es la segunda

la culpa nunca es mía la culpa siempre es del de fuera quién tiene la culpa de la situación de precariedad laboral en euskadi pues la culpa es del gobierno y de la reforma laboral

dos noticias con titulares muy parecidos esta la precariedad laboral retrasa la emancipación

los titulares son muy parecidos muy parecidos saben cuál es la diferencia entre los dos la fecha

cuando algunos en euskadi presumían de que aquí no había crisis y la segunda es de octubre del dos mil quince antes dela demonizada última reforma laboral también en euskadi existía precariedad laboral y cuál es el punto en común entre las dos iniciativas que en los dos momentos

nacionalista vasco y es que la temporalidad y la dificultad de acceso al mercado laboral de la población en general y de los jóvenes en particular ha sido una constante a lo largo de los últimos veinte años se ha dicho aquí cómo estamos

que las comunidades autónomas que menos tasa de temporalidad tienen son la comunidad de madrid o de la rioja

a la comunidad de euskadi que tiene un veintitrés casi un veinticuatro por ciento de temporalidad de hecho si de la serie nacional eliminamos el dato de otras comunidades autónomas que por su modelo económico

temporalidad nos encontramos con que en euskadi existe un alto

y es la satanizada reforma laboral del gobierno del partido popular la culpable de la precariedad y la temporalidad como parece que vino a decir el señor toña hace una semana

prácticamente todos los partidos todos los medios de comunicación le imputan todo la precarización de las condiciones laborales la reducción de los salarios e incluso la elevada tasa de paro

no voy a volver a explicar lo que hemos debatido con profusión que el mercado español el mercado laboral español tenía una serie de problemas estructurales que era necesario encauzar pero más allá de lo que puedan decir algunas de las terminales mediáticas próximas a la izquierda una de las cosas que buscaba esa reforma laboral precisamente era acabar con la tendencia generada por otra reforma laboral

hizo una reforma laboral con huelga general incluida por cierto reforma

se abstuvo y en esa reforma había una concatenación de contratos temporales es decir se vivía en un contrato temporal permanente y la reforma laboral pretendió

introdujo incentivos para potenciar la contratación de jóvenes de parados de larga duración y de personas con cargas familiares priorizó el apoyo a las pymes

es verdad que los contratos temporales en euskadi y en el resto de españa deben ser disminuidos pero eso no tiene

del mercado laboral porque me quiero referir aquí a que es verdad que tenemos que hacerle frente tanto a la temporalidad tanto a los parados de larga

a las tasas del empleo de las mujeres pero realmente cómo podemos hacerlo con la propuesta que hoy se presenta aquí y poniendo un fondo adicional de quinientos millónes se soluciona pues nosotros consideramos que

muchas más medidas que esas no solo la aprobación de la ley de empleo es necesario invertir

valor añadido y creemos también que debe hacerse con rigor porque aquí también se ha dicho y en la interpelación se ponía de manifiesto

era de las manifestaciones que el lehendakari había hecho para acabar con la austeridad y el déficit más allá de que podamos compartir que

no es menos cierto que debe hacerse desde posiciones de un gobierno serio y responsable y ello pasa por no irse al extremos contrario es decir a gastar sin control lo que no se tiene porque ello es lo que ha llevado en buena medida a la situación que hemos vivido desde el año dos mil siete y de la que todavía a día de hoy no hemos conseguido recuperarnos porque una cosa como digo es rebajar las políticas de austeridad y otra bien distinta

porque al final el déficit público hay que pagarlo y casi siempre se paga del mismo modo

y las instituciones claro que pueden solicitar un incremento de las cifras de déficit permitido pero hasta que eso no cambie

las cifras de ese déficit y lo que viene a solicitar la proposición es que nos saltemos esas cifras que nos saltemos el rigor

muchas más cuestiones y suponemos como digo que sería incrementando la deuda pública porque si es reduciendo partidas que están en el presupuesto también habría que explicar

para sacar ese fondo adicional de quinientos millónes porque el dinero del aire la verdad es que todavía

y llama también la atención y con esto acabo que habiendo gobernado el partido proponente en otras instituciones sin embargo

en esas instituciones se han respetado las cifras del déficit igual que se han respetado otras normas por mucho que en otras cámaras

recuerdo emocionado a los trabajadores fallecidos en el accidente laboral de ondarroa y

bien respecto de la iniciativa de euskal herria bildu decirle señora arrondo empezando por el final nosotros no podemos suscribir su propuesta porque como sabe toda la cámara tenemos un acuerdo presupuestario con el gobierno

suscribir un acuerdo de esos excedería en mucho los términos de esos acuerdos por otra parte la cifra que ustedes manejan

en el papel que lo aguanta todo podían haber puesto esa cifra o cualquier otra y nos parece desde luego

sino de política y en lo que sí estamos de acuerdo

el tema de la precariedad junto con el paro se ha convertido a día de hoy

sociales políticas laborales y demás bajos salarios temporalidad ausencia de reconocimiento profesional en fin hay una serie de hechos que muestran llamamos precariedad hoy en día que no es más que la reducción de las obligaciones empresariales y traslación del riesgo empresarial al mundo del trabajo al mundo de los asalariados esto efectivamente ocurre como consecuencia de un proceso histórico determinado no ocurre por casualidad y ciertamente constituye un fenómeno general que no afecta solo a nuestro ámbito sino que

como sacan el tema de la precariedad nosotros los socialistas tenemos una serie de propuestas que hemos planteado y de las que le voy a hablar ya que el tema se ha suscitado para nosotros los socialistas algunas de las medidas que planteamos que pueden

fenómeno de la precariedad empiezan por plantear tres tipos de contratos contrato indefinido contrato temporal y de relevo planteamos también

temporales y que ningún contrato temporal pueda durar más de un año aunque por negociación colectiva pudiera ser ampliable a dos tratamos también de llevar adelante políticas

acabar con los falsos autónomos con los falsos becarios incremento salarial del salario mínimo interprofesional hasta el setenta por ciento del salario medio neto lucha contra la brecha

nueva regulación del trabajo a tiempo parcial y por supuesto revitalizar la negociación colectiva la negociación colectiva para los socialistas tiene un carácter también de

y la negociación colectiva pues en fin no vive sus mejores días señaladamente en nuestro territorio

la lucha contra la precariedad laboral se plantea como una lucha

determinado por un proceso histórico y entonces cómo paliar cómo paliar con qué políticas paliar esta lacra de la precariedad

el argumento sobre el cual deviene la precariedad es el de la flexibilidad laboral

ha devenido en todo esto entonces nosotros creemos que el argumento de la flexibilidad puede tener algún carácter en fin atendible pero que

absoluta desregulación del trabajo de las relaciones laborales y que finalmente traslada el riesgo empresarial a los trabajadores nosotros hemos planteado en ese decálogo una serie de medidas pero también es verdad que desde el gobierno vasco

nosotros hemos dicho reiteradamente que en materia de políticas de empleo el gobierno

merece un suspenso y hemos señalado en otros asuntos algunos déficits importantes pero en

a bote pronto medidas que se pueden

sería por ejemplo como ya señaló nuestra portavoz en esta materia la señora sánchez dotar las plazas que faltan de la inspección de trabajo eso es muy importante

de unas relaciones laborales absolutamente despóticas absolutamente fuera

retrógrado que sea y por lo tanto la presencia de la inspección de trabajo es importante y

ha desatendido la necesidad de cubrir esas plazas otros aspectos que también podrían considerarse por ejemplo en las obras la presencia continuada de los delegados de prevención y de los coordinadores de seguridad que normalmente van por allí hacen una visita y se marchan porque claro no hay que olvidar que otro elemento

consecuencia de la precariedad es también el aumento de la siniestralidad laboral el aumento de la siniestralidad laboral tiene mucho que ver también con la precariedad

los delegados de prevención y la inspección de trabajo haciendo su trabajo podrían ser así sin ir más lejos medidas que el gobierno podría tomar seguidamente para

combatir algunos de sus efectos más perniciosos por lo tanto como digo

de medidas que creemos que pueden contribuir a combatir este fenómeno de la precariedad posiblemente no a erradicarla porque

no parece fácil sin embargo

lo que sí venimos defendiendo también es la necesidad de una cobertura social suficiente para que

fácil transitar contra esta nueva doctrina de la flexibilidad laboral

sí por lo menos que eso no suponga desamparo para los trabajadores ni inseguridad ni

una potente red de cobertura social sería otra de las medidas nosotros la tenemos naturalmente que sí pero seguramente que contra el fenómeno de la precariedad que tiene ya caracteres

haría falta efectivamente que esa red de protección social

fuera suficiente red para minimizar los efectos de la precariedad como digo nosotros tenemos algunas de esas medidas

el gobierno de españa pase por la presencia de los socialistas en ese punto nosotros con ese decálogo que hemos planteado

al principio entendiendo que el debate que usted plantea que no es la primera vez que se trae aquí que es interesante que efectivamente es un debate de nuestro tiempo pero

ikus ditzakegu langabezi tasa beherantz doa apurka apurka en febrero el número de desempleados bajó en doscientos treinta y siete personas cifra pequeña pero que refleja una senda en positivo que viene acompañada por un incremento del número de afiliados en la seguridad social

el gobierno desde el primer día ha venido trabajando por conseguir mejorar la situación por crear las condiciones que faciliten la creación de empleo para ello impulsó el plan de empleo dos mil catorce dos mil dieciséis con setecientos setenta y cinco millónes de euros comprometidos en tres años que complementan un plan de reactivación económica

como las correspondientes partidas económicas es cierto que las modificaciones laborales aprobadas a instancias del partido popular en el congreso de los diputados

permiten modalidades contractuales que carecen de estabilidad y duración en el tiempo lo que a su vez genera inseguridad

es verdad que la reforma laboral impulsada por el partido popular no ha ayudado a la creación de empleo ha creado situaciones de mayor inestabilidad respecto al gran número de trabajadores y trabajadoras que están sin convenio al que usted hacía referencia en su interpelación es de justicia recordar que independientemente de la reforma laboral

en euskadi por lo tanto también que cada cual asuma su responsabilidad lan araudia estatuaren eskumena dela

baina legeak bete behar direla ere argi daukagu para crear empleo de calidad hay que empezar por crear empleo supongo que estará de acuerdo con nosotros en esta premisa y en ello está el gobierno

buscando las condiciones que mejoren el empleo de calidad programas plurianuales que incluyen planes locales y comerciales

con prácticas incentivación a la contratación de mayores de cuarenta y cinco años

usted bildu hizo suyas las ideas manifestadas por el lehendakari urkullu en el foro

dos mil veinte relativas a la petición a la unión europea para que replantee su política de austeridad que nos ahoga que puede hacer dos mil diecisiete presupuestariamente muy complicado

más demandas de políticas sociales más y mayores exigencias límite de deuda y cumplimiento del déficit y todo ello con menos recursos necesitamos disponer de capacidad financiera para proyectos estratégicos y de innovación palabras del discurso del lehendakari en la universidad de deusto que usted

berea egiteagatik y aquí discrepamos señora arrondo

viene manteniendo esa misma postura desde hace tiempo mucho tiempo en el foro económico y mundial delante de todos los mandatarios europeos

su discurso fue en la misma línea mientras algunos criticaban la participación del lehendakari en dicha cumbre y otros se dedicaban a destruir todo el mobiliario urbano que encontraron a su paso el lehendakari insisto dejó

que solamente las medidas de austeridad no eran suficientes que eran contraproducentes para salir de la crisis

que favorezca a su vez la creación de empleo lehenengo enplegua sortu behar da enplegu gabe ez dagoelako enplegu kalitateari buruz

zein kontu egin dituzue horrelako kantitatea eskatzeko no parece que se haya realizado ningún análisis riguroso para pedir dicha cantidad ni se explica

de dónde piensan que se pueden obtener esos quinientos millónes adicionales zuekin bat gatoz lan baldintzak hobetu behar direla guztion artean

eta gero horrelako proposamenen aurrean kontra bozkatzea no son cosas de comer de las que estamos hablando no es una iniciativa posible y que mejoraría por lo menos en unos sectores concretos algo de la situación nefasta que se está viviendo en este momento cómo puede ser porque lo estamos leyendo estos días

que su partido es el único partido parece centrado en el paro la sanidad y las pensiones

no sé donde estamos y que luego cuando se hagan propuestas concretas para mejorar y dar soluciones y buscar salidas a sectores que lo están pasando francamente mal el partido socialista dice que como tiene un acuerdo

con el gobierno con el partido nacionalista vasco no puede dar un paso hacia adelante eso también merece algún que otro calificativo eta

señora arrondo es que hay muchas forma de hacer demagogia muchas

la verdad es que eh bildu hace demagogia y con esta iniciativa hace demagogia en esta cámara total y absolutamente

gobierna o ha gobernado hace una cosa diferente hace cosas diferentes

decir que las cifras de déficit cuando el que gobierna es otro se pueden alterar se puede caer en rebeldía se pueden no cumplir y sin embargo en las instituciones en las que uno gobierna ni planes ni saltarse las cifras del déficit porque

que se pueden negociar para que las políticas de austeridad se vean modificadas pero en cualquier caso tampoco podemos ir a una ampliación del déficit sin límite porque los déficit como digo después hay que pagarlos y gran parte de la situación en la que estamos

se debe precisamente al ingente gasto público que se hizo en el gobierno de españa durante mucho tiempo

de la vuelta del partido socialista y la generación de empleo

qué quiere que le diga precisamente ustedes un seguro para generar empleo no son

ya lo siento pero es que el señor zapatero cogió el desempleo

y lo duplicó hasta una tasa del veintidós por ciento cogió españa

luego ustedes la verdad es que como seguro para generar empleo pues no sé yo y como seguro para ir en contra de la flexibilidad tampoco lo sé porque parece que la reforma laboral le nombrado antes una la del señor zapatero que el partido nacionalista vasco se abstuvo pero es que ha habido más ha habido muchas reformas laborales

y esa fue una de las reformas laborales más intensas que hubo que se hizo sin la participación de las centrales sindicales

normativa de contratación y en la negociación colectiva se facilitó a las empresas una nueva herramienta con el incremento de causas para los despidos por causas tecnológicas o económicas y se permitió crear un nuevo contrato de aprendizaje que a partir de ese momento fue conocido

luego eso de que todas las reformas laborales

son solamente las del partido popular pues ya ve que no que ha habido muchas y hechas por ustedes

de la flexibilización del mercado laboral no voy a volver a hablar de la reforma laboral y de la flexiseguridad porque hemos debatido profusamente pero mire

de desempleo y de ocupación a los países de europa y son precisamente en esos países en los que los mercados están más liberalizados y precisamente de donde son un ejemplo de la flexiseguridad y de la flexibilización del mercado laboral y precisamente es donde tienen empleos más estables porque tienen empleos más estables y desde luego tienen índices de paro menores luego una cosa no tiene que ver con la otra necesariamente por mucho que ustedes

ni tampoco tiene que ver la flexibilidad con un aumento de la siniestralidad laboral no lo que habrá que hacer es precisamente

siniestralidad laboral y ya por ultimo me referiré al partido nacionalista vasco que yo sí estoy de acuerdo con algunas de las manifestaciones que se han hecho aquí y es que ha sido una legislatura absolutamente mediocre en la creación de empleo

al partido nacionalista vasco se le llena la boca siempre hablando de autogobierno y cuando tiene herramientas para ejercer ese autogobierno cuando tiene herramientas para poder actuar en el mercado laboral no lo ha hecho y de hecho hemos estado por detrás en la generación de empleo toda la legislatura del resto de españa y usted me podrá sacar igual los datos del dos mil quince que son en los únicos

hemos creado menos contratación hemos tenido menos contrataciones que la media española y el paro ha aumentado también dos puntos más que la media española

está visto que el partido nacionalista vasco cuando gobierna con el viento a favor puede sacar unos resultados pero desde luego no sabe gobernar cuando el viento arrecie y cuando el viento va en contra y esta legislatura desde luego ha sido

bueno señora llanos visto que a usted le gusta acudir a la historia

voy hacer yo también un poco de retrospectiva verá ustedes han conseguido convencer sin duda alguna

bien tengo que reconocerles que es un éxito dialéctico por su parte pero tengo que recordarle ya que usted apela a la historia

la principal institución financiera mundial el fmi decía que los fundamentos de la economía mundial eran sólidos

y las políticas de zapatero se basaban ese tipo de dicterios

quiere que se lo diga un piernas un piernas y ese señor era el que gerentaba la principal institución financiera mundial que venía a decir a todos los gobiernos occidentales que los fundamentos de la economía iban

se demostró que todo eso era como todo lo que ha rodeado a ese señor

una gran mentira por lo tanto usted hace bien en utilizar ese argumentario muy adecuado para incautos pero quiero decirle que por lo menos a mí esa historia de que zapatero fue el que trajo la crisis mundial

no va a entrar señora arrondo yo a diferencia de ustedes no pongo en duda de que ustedes están comprometidos con la precariedad ustedes ponen en duda que nosotros lo hagamos pero yo no tengo duda lo que quiero decirle o que trababa de decirle en la primera intervención es que no es una cuestión de voluntarismo

sin embargo usted lo que no ha hecho es plantear exactamente

pese a discrepancias de fondo por ejemplo cláusulas sociales en la contratación y otras que forman parte de una gran cesta de medidas yo he citado un par de ellas porque en fin efectivamente aquí

que pasan por de pronto lo de la inspección o tal son cosas que me venían a la cabeza

su propuesta de lo que adolece es de falta de medidas concretas y lo entiendo

extensa y mucho más compleja que resolver con cuatro ocurrencias entonces lo que plantean es algo que yo pues en fin he visto con bastante profusión en política sobre todo a veces los grupos más minoritarios para hacerse notar bueno pues hago una propuesta

en magníficos valedores las políticas tienen que ser posibilistas nosotros no defendemos la precariedad y cuando he dicho en la primera intervención

no estoy eximiendo a ningún gobierno estoy diciendo que efectivamente ha habido modificaciones normativas ha habido en definitiva una involución en el derecho laboral eso es evidente y seguramente nosotros y

pues porque los dogmas neoliberales se han impuesto con tal amplitud que efectivamente

de ese tipo de doctrinas pero eso no quiere decir que no tengamos conocimiento ni conciencia clara de donde están los problemas y por dónde pueden ir algunas vías de solución que atajen que vayan paliando estos problemas teniendo en cuenta efectivamente que y además debo decirle otra cosa

una cruzada pero ustedes precisamente debieran de saber que soberanos son los países acreedores no los países deudores y por lo tanto en fin el déficit no es algo que pueda asumirse

también deben de recordar y de saber que una forma de colonización moderna es endeudar precisamente a países y a regiones enteras por lo tanto hay que tener

un cierto criterio para saber hasta dónde llega que están comprometidos en la lucha contra la precariedad yo creo que sí pero créame nosotros también

hobeagoa izango genukeela pues implícitamente está reconociendo

el señor urkullu las hace mucho mejor que en el resto del estado

al partido popular decía

en toda la legislatura en la generación de empleo sí y lo repetían una y otra vez cada vez que teníamos un debate relacionado con temas de empleo últimamente

porque precisamente la situación está mejor mejor lleva bastante tiempo por delante del estado no hay más que ver los niveles de tasa que hay en el estado los que hay en euskadi

la señora arrondo etcétera etcétera por lo tanto lecciones las mínimas sigan

que aquí nos autogobernaremos muchísimo mejor cuando las competencias estén en manos del gobierno vasco mila esker eskerrik asko arregi andrea eztabaida amaitu denez

vamos a empezar hoy con un asunto que para un observador ajeno al asunto de la prescripción enfermera modificada por el decreto novecientos cincuenta y cuatro barra dos mil quince

al contenido del decreto y de los puntos que no nos parecen acertados pero después de comparecer los representantes de los colegios de médicos de los colegios de enfermeras de los sindicatos en comisión y de relaciones bilaterales con todos ellos

el decreto recoge lo peor de cada casa es decir

generales más arriba de determinados colegios generales pero no de los colectivos a quienes representan deben de ser intereses de poder

sin siquiera estar casados ambos planos el resultado es un decreto que no gusta a nadie ni siquiera a los que han metido mano en él

pero como este paso ya lo hemos dado el de rechazar el decreto lo hemos analizado y ya lo hemos rechazado lo ha rechazado el parlamento vasco el gobierno vasco el consejero de hecho

un recurso los colegios de enfermería lo han rechazado también los sindicatos y qué dicen los colegios de médicos pues que algunas cosas les gustan pero en general no les gusta

porque además genera problemas donde no los había y cuando un decreto consigue una respuesta de adhesión ferviente o de rechazo ferviente es que no está ajustado que algo falla en él y como digo qué les gusta a los representantes de los colegios médicos

que tanto el diagnóstico como el tratamiento o la prescripción médica corresponde al médico el resto lo rechazan y reconocen que además

que se les exija unos cursos de ciento ochenta horas para prescribir

aconsejar el vecino por ejemplo tómese usted un paracetamol aconsejar el camarero del bar pero no la enfermera si no ha hecho esas ciento ochenta horas por lo tanto este decreto como digo

para los médicos que ya habían acordado con las enfermeras

en el cual las enfermeras podían realizar funciones como por ejemplo el control de los enfermos crónicos valorando la situación

originalmente por un médico que podían ajustar las dosis y eso ahora les impide el decreto otra cosa que también genera conflicto entre equipos de médicos y enfermeras que hasta ahora eran pacíficos y que como digo compartían espacio y tratamiento

del calendario vacunal infantil porque así como en otras propuestas de vacunas

autoridad sanitaria que lo plantee y que por lo tanto no necesita una prescripción individualizada en el caso del calendario infantil ya está generando problemas porque las enfermeras no se sienten con capacidad jurídica suficiente para decidir ellas que pueden poner unas vacunas que no ha prescripto el médico y que no ha habido ninguna

que lo ha prescrito y que por lo tanto no tienen seguridad jurídica para hacerlo ese es un área en este momento sin resolver como digo se están generando problemas concretos en áreas bastante importantes

qué soluciones se proponen aquí el consejero hasta ahora ha señalado a las direcciones de enfermería y de

que no pasa nada que el real decreto da un periodo de cinco años

como digo para prescribir lo que no necesita prescripción para aconsejar a un paciente unas tiritas unas gasas unas vendas

hoy como digo puede prescribirlo cualquier vecino entonces tiene el consejero razón pues aquí hay un problema porque el consejero dice que no pasa nada pero los informes jurídicos de los colegios de enfermería dicen y de otros sindicatos también el abogado del estado que esto no se resuelve con una póliza de responsabilidad civil que aquí puede haber responsabilidades penales individuales

esta la respuesta ante una denuncia o un efecto adverso que los hay cuando uno pone un tratamiento

asegura personalmente de que efectivamente él

van a asumir cualquier responsabilidad que se presente con motivo

de esta interacción y que claro es que

civil le han dicho al consejero que no asumen esa responsabilidad entonces

la responsabilidad de la póliza civil no se lo habrá dicho al consejero pero se lo ha dicho a otros interesados que tenían también póliza con la casa zurich ya sabemos que ahora hay otra casa

por el desarrollo de competencias que teóricamente no están avaladas en el decreto y por lo tanto le décimos al consejero que

por tanto quien tiene la responsabilidad de resolver este problema

esta problema que como digo está generando consecuencias

de médicos y por consecuencia en el colectivo de pacientes tiene que decirnos él cómo cree que se debe de resolver este problema porque hacer como que no hay decreto no vale hacer como que no hay decreto no sirve salvo que usted quiera cosa que no suele ser habitual es usted dada su prudencia decidir tirar por la

o hacer un enfrentamiento con madrid directo e incumplir el decreto los médicos nos han sugerido en comisión

un listado de medicamentos que pudieran

pero es que ese listado no era como listado sí como actuación

no sé si el consejero está dispuesto a trabajar con el colectivo d enfermeras y de médicos para acordar un listado de medicamentos que pueden ser dispensados por las enfermeras

a responsabilidad penal lo que le pedimos al consejero es que nos diga qué solución cree él que se debe plantear en euskadi

cómo lo hacen otros otros tendrán la responsabilidad que les toque con sus

en este caso en este caso en euskadi la responsabilidad como nos recuerdo siempre el consejero es del consejero díganos díganos

cómo va a resolver este problema que todos reconocen que ha creado el real decreto

médicos enfermeras sindicatos parlamento todos reconocemos que ha habido un problema que ha generado la aprobación del real decreto

es el gobierno vasco y el gobierno a través de su consejero de sanidad nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal andrea

como decía un buen amigo el mejor gobierno que podemos tener en el estado español

por lo menos cuando está en funciones en dicho periodo tenemos

y demás recortes e intrusismo en nuestras limitadas competencias soberanía la última legislatura ha sido un despropósito

noski madrilek eragotzi arren eta madrilek nahi izanez arren aunque madrid intente impedirnos y aunque madrid no lo quiera

genuen decía que no es la primera vez que hablamos de esta cuestión del contenido

la indicación uso y la autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros esa cuestión

ocupó parte de las intervenciones y del debate que se sustanció en esta cámara pero fue a propósito de una iniciativa planteada por el partido socialista en relación al papel de la enfermería nosotros desde luego estamos absolutamente de acuerdo con esa iniciativa inicial y dimos como grupo popular nuestro ok a la elaboración

de enfermería por entender que el papel de enfermería es un papel relevante

asistencial en el ámbito de la atención primaria lo que tiene que ver con prevención promoción de la salud y rehabilitación y también en el ámbito de la atención especializada lo que tiene que ver con las urgencias y también lo que tiene que ver en otro ámbito que se está potenciando mucho

atención a los enfermos crónicos a los enfermos pluripatológicos

la continuidad de cuidados a estos enfermos por lo tanto creo que también

profesional dentro de todo el proceso asistencial y así creo que también lo defendimos en el debate de esta iniciativa y que es necesaria la coordinación también de los diferentes niveles asistenciales

el partido socialista trae una iniciativa a consecuencia también de una interpelación

pero yo sí que pensaba que viendo el objeto de la interpelación está más dirigida a la misma y la moción

roncal que es el objetivo de la misma puesto que ya ha habido un pronunciamiento en la cámara citado real decreto digo que el objetivo era más de alguna forma censurar o reprochar o corregir ciertas actitudes por parte

siendo conformes al cumplimiento de una normativa en vigor como puede ser este real decreto voy a hacer unas breves referencias puesto que se han hecho aquí al contenido del real decreto con este real decreto

odontólogos y podólogos ahí no ha habido ningún cambio esto es así

en el ámbito de sus competencias también como ya se preveía en la ley

en dos tipos de actuaciones nosotros entendemos que hacía falta una regulación

y es de alguna forma lo que trata de subsanar el real

tiene que intervenir como lo ha hecho hasta ahora el médico y productos sanitarios mediante una orden de dispensación y también que esta facultad

médica una vez que se regule la aplicación de protocolos guías y práctica asistencial de elaboración conjunta acordados por las organizaciones colegiadas de médicos

no me voy a centrar en todo el contenido del real decreto sí quería decir que el colectivo de

ahora previa acreditación de la competencia de uso e indicación de medicamentos no sujetos a prescripción médica y de productos sanitarios que ahora no estaba reconocido y que

la competencia de indicación y uso en medicamentos sujetos a prescripción médica se establece teniendo en cuenta la seguridad del proceso y del paciente está protocolarizada y requiere de las instrucciones de tratamiento que deben figurar en la historia clínica según la ley cuarenta y uno barra dos mil dos de autonomía del paciente

queda claramente delimitado el campo de actuación y de las competencias de ambos profesionales que se ha intentado mejorar la situación legal

del personal de enfermería y que sin duda esto contribuye a mejorar la seguridad jurídica de los profesionales tanto de los profesionales como de los pacientes en todo el proceso que se regulan como he indicado aspectos que no estaban regulados y que la regulación de la indicación y uso de la autorización de la dispensación médica era una demanda histórica por lo tanto creo

quede aclarado el tema de la gripe porque fue objeto de discusión en el anterior

se va a desplazar a un país en el que puede haber un riesgo epidemiológico se va al médico y el médico hará un diagnóstico correspondiente y prescribirá

y creo que hay que diferenciarlo bien de una campaña de vacunación creo que hoy ha quedado eso claro como puede ser la gripe en el que hay un riesgo epidemiológico y hay una instrucción clara de la autoridad sanitaria y por lo tanto cuando hablamos de una campaña de vacunación como puede ser la gripe la decisión parte de la autoridad sanitaria ya hay un riesgo epidemiológico detectado con el objeto de preservar la salud pública por lo tanto no se requiere

de enfermos pues ya se han identificado los cohortes más expuestos a ese hipotético riesgo también tengo que decir que todos sabemos de la noticia de la denegación de la suspensión cautelar de este decreto y del artículo

del artículo tres punto dos y según la resolución correspondiente esta ha sido denegada

aparte de que obviamente cada grupo tenga una posición sobre el real decreto

debate yo creo que nos trae aquí una cuestión importante y creo yo por lo menos que era el objetivo inicial también de la proponente puesto que lo otro ya era un debate zanjado y ya sabíamos las posiciones es una vez

del gobierno vasco y del consejero al frente del departamento que ha tenido en relación al colectivo

de pacificar se ha podido contribuir de alguna forma

en un ámbito en el que no tenía que haber controversia porque ciertas comunicaciones del departamento de salud

colectivo de enfermería a seguir actuando como si no hubiera pasado nada y como si no se hubiera aprobado una normativa con un contenido específico creo que no es para nada apropiado y creo que ha sometido a un colectivo injustamente a una

y a una conflictividad o a una tensión absolutamente innecesaria y creo que eso sí que es censurable desde luego nosotros queremos hacerlo hoy en esta tribuna y de acuerdo a esta posición

de transacción parece mentira que una enmienda de transacción se tenga que instar al gobierno a esta serie de cosas pero nos hemos visto obligados y de alguna forma también recogiendo

el fondo del objetivo de la iniciativa inicial instamos al gobierno vasco al estricto cumplimiento del real decreto obviamente es el que está en vigor y sabrá muy bien el lehendakari que las normativas los reales decretos las leyes mientras no se cambian son las que están

a cumplirlas y por otra parte instamos al gobierno vasco más concretamente al departamento de salud del gobierno vasco y se lo décimos muy claro en un párrafo

como digo instamos al departamento de salud del gobierno vasco a que se abstenga de adoptar cualquier medida

acciones que puedan suponer la vulneración de la legalidad o incurrir en la comisión de ilícitos que den lugar a las consiguientes responsabilidades penales la terminología es jurídica pero creo

lo que estamos conociendo y la actuación del departamento este párrafo tengo que decir que en principio no sé si va a haber algún receso

roncal y con algunos otros grupos también hay una enmienda pero a mí todavía no me ha llegado no tengo conocimiento

esperaré a conocerla pero bueno yo espero que de este parlamento puesto que ya hay un pronunciamiento sobre el real decreto

a un compromiso del gobierno y del departamento de sanidad de respetar escrupulosamente la normativa vigente eskerrik asko garrido andrea mistoa

gracias presidenta buenos días de nuevo vaya por delante que apoyamos al gobierno vasco en su decisión de interponer recurso

el decreto novecientos cincuenta y cuatro barra dos mil quince de veintitrés de octubre por el que se regula la indicación uso y autorización de medicamente y productos sanitarios de uso humano

enfermeros es un real decreto que no compartimos como consecuencia de su aprobación las enfermeras los enfermeros son en este momento un colectivo

subordinado y al servicio de los médicos que no puede adoptar prácticamente ningún tipo de decisión ni suministrar ningún tipo de medicamento se trata de una decisión del gobierno de españa que no tiene en nuestra opinión ningún tipo de justificación y que sencillamente no se entiende por lo tanto nos oponemos al real decreto pedimos su derogación o su corrección ante la cura de una herida

antibiótica o determinados geles o apósitos que llevan metales u otros componentes medicamentos

esto queda anulado la enfermera o el enfermero solo podría poner una venda y aplicar antiséptico algunos dudan

optar por uno u otro implica una prescripción el real decreto obliga a que sea el médico el que diga cómo ha de hacerse la cura y que se debe aplicar el problema

enfermeras habitualmente aplican de forma habitual por su cuenta y sin consulta médica

ayudar a respirar ante dificultades respiratorias etcétera todo eso no pueden hacerlo desde la entrada en vigor

osan dispensar algún tratamiento por básico que pudiera ser pueden encontrarse con una demanda la oposición al real decreto la compartimos todos

el asunto es que el señor consejero insiste en que

sigan desarrollando las tareas que venían realizando antes de la aprobación del real decreto durante la interpelación realizada por la señora roncal

obligado cumplimiento sin embargo insistió también en que no hay problemas jurídicos

el consejero nos informó de que envió un escrito a todas las direcciones de los centros públicos privados mutuas y centros sanitarios para que todo el personal

supieran cómo no dejar de aplicar el real decreto sino interpretar su aplicación correctamente

el señor consejero de manera literal además el consejero señala señaló que el gobierno vasco dispone de un informe jurídico que avala

ese informe jurídico el asunto es sensible señor consejero por lo que le pedimos a usted

que no actúen de manera irresponsable porque además el abogado del estado ya señaló que la actuación de las enfermeras prescribiendo medicamentos sin competencia legal supone

intrusismo por lo tanto señor consejero nosotros le pedimos que actúe de manera responsable en fin que no

o a las enfermeras usted señaló que disponemos de los resortes legales necesarios para que a pesar de la situación generada por el real decreto sigamos prestando un buen servicio con calidad y seguridad para los pacientes y también

para los profesionales algo que reivindica también el grupo nacionalistas vascos en su enmienda de totalidad registrada señor consejero si este parlamento vasco le pide que cumpla lo señalado en ese real decreto y que no ponga en riesgo a las enfermeras la responsabilidad será solo suya y de su gobierno

donde efectivamente se recoja esto pero creo que es evidente que más allá de que estemos en contra de ese real decreto como una mayoría de esta cámara lo está es evidente

a los enfermeros o a las enfermeras entiendo que usted señor consejero no es un irresponsable y que actuará en consecuencia es decir de manera

profesiones sanitarias donde se establece que en el ejercicio profesional se soporta en guías y protocolos de actuación vino a decir que

que las enfermeras pueden hacer determinadas actuaciones estarían perfectamente cubiertas y no existen más riesgos que antes del real decreto usted dijo esto está convencido se le ve muy convencido nosotros en todo caso lo dudamos también es verdad que responsabilidad que efectivamente esto se haga así tampoco vamos a pensar nosotros que usted es

evidentemente por otro lado es cierto que se sigue trabajando de forma similar a como se hacía antes del real decreto y que de momento no ha habido ningún problema esto también es cierto de momento no ha habido ninguna problema no queremos que haya ningún problema pero en todo caso jugar con fuego y cumplir estrictamente todas las leyes vigentes las que nos gustan y las que no nos gustan entendemos también que el panorama es complicado

podría provocar un lío en la sanidad puesto que casi cada cosa que fuera a hacer una enfermera primero tendría que estar prescrita por un médico lo que llevaría prácticamente al colapso de las consultas de atención primaria y en muchos servicios hospitalarios mientras que incumplir evidentemente

a las enfermeras en fin señor consejero le pedimos por lo tanto máxima transparencia y responsabilidad

y votar nuestra enmienda de totalidad en la que proponemos que este parlamento

a derogar o corregir el real decreto novecientos cincuenta y cuatro barra dos mil quince de veintitrés de octubre y en la que proponemos instar al gobierno vasco a cumplir evidentemente y estrictamente este real decreto mientras se encuentre vigente

y de las enfermeras en el ejercicio de sus tareas creo que proponemos algo razonable no llamamos a la rebelión no pedimos

seguridad jurídica mientras ese real decreto

helburua edo zioa realmente no acabamos de entender bien el objeto de esta moción ya en la propia interpelación sobre el cumplimiento del real decreto novecientos cincuenta y cuatro barra dos mil cinco de la que nace esta moción hay algo que no cuadra

deducimos que el planteamiento de la cuestión es confuso cuando menos en la iniciativa inicial usted afirmaba que el consejero de salud había enviado una comunicación

de la necesidad de seguir prescribiendo como hasta la fecha e instándoles a obviar la regulación contenida en el real decreto

no sé de dónde saca usted esa información porque desde luego no es lo que recoge

vuelve a insistir en esa idea en el pleno de control donde se sustanció la interpelación

a las profesionales de enfermería que no existe transitoriamente la obligación de cumplir el real decreto e incluso añade de su propia cosecha

el colectivo de enfermería no debe cumplirlo realmente un ejercicio de manipulación de las palabras sorprendente pero desde luego que en ningún modo es lo que les decía el consejero en su escrito pero es lo que es aún más llamativo es la justificación de la moción que hoy debatimos

no especificó su política sobre el cumplimiento del real decreto y le insta al gobierno vasco al estricto cumplimiento del mismo mientras no sea derogado roncal andrea

así se lo confirmó el propio consejero a su pregunta literal considera que hay obligación de cumplir el real decreto sí o no considera que hay que cumplir el acuerdo parlamentario del cuatro de febrero para que el gobierno vasco utilice todos los medios legales y normativos

eta ari diren aurrera eramaten y en ese sentido le recuerdo que entre otros ya el treinta de diciembre del año pasado se envió un escrito

tanto públicos como privados en relación con el real decreto para que todos tuvieran instrucciones precisas de cómo nos iba a afectar a partir de su entrada en vigor eta hori guztia

nahiz eta garrido andreak pistaren bat eman digun el gobierno lo ha dicho claramente el real decreto está en vigor y esto es incuestionable la única que parece cuestionarlo es usted o es que todavía no está convencida de que está en vigor

incluso después de que el consejo de estado hubiera emitido su informe perceptivo se modificó el texto del real decreto

señora garrido no hace falta que haga de bombera pirómana porque como usted ha dicho las tensiones los problemas las disfunciones no los crea este gobierno

por lo tanto entendemos que no es necesario que usted haga de bombera pirómana usted sabe señora roncal que el real decreto novecientos cincuenta y cuatro establece un régimen transitorio

uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano

dicho régimen transitorio es de cinco años a contar

de diciembre del año dos mil veinte sabe que además

por parte de las enfermeras y los enfermeros de medicamentos sujetos a prescripción médica

hay que nombrar representantes entre otros de las comunidades autónomas para que participen en su elaboración la comisión permanente de farmacia del consejo interterritorial del sistema nacional de salud y que luego

hay un periodo transitorio para llevar a cabo todo eso pues bien eso

una y otra vez está en vigor y es de obligado cumplimiento hau da bost urteko epea akreditatzeko

y mire si en sus disposiciones derogatorias dice algo al respecto

ya identifica los criterios para estimar la adecuación de los protocolos y en su artículo cuatro dice

basándose en la evidencia científica y en los medios disponibles y soportados en guías y protocolos de práctica clínica y asistencial

y los protocolos deberán ser utilizados de forma orientativa como guía de

esta ley no ha sido derogada por lo tanto los protocolos existentes tienen plena

a las y los profesionales que se acogen a ellos la aplicación de los mismos no implica ningún riesgo en cuanto a responsabilidades civiles o penales a las que usted aducía el decreto treinta y ocho barra dos mil doce de historia clínica también está en vigor el real decreto no la ha derogado por lo tanto el real decreto novecientos cincuenta y cuatro está en vigor la ley cuarenta y cuatro barra dos mil trece de ordenación de las profesiones sanitarias está en vigor el decreto treinta y ocho barra dos mil doce

el real decreto legislativo uno barra dos mil quince por el que se aprueba el texto fundido de la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios está en vigor ondorioz existitzen da

del mismo pero tampoco el real decreto en su conjunto porque no respeta nuestras competencias y no estamos de acuerdo en que los protocolos se validen en madrid

si mi discurso es correcto y adecuado no veo la contradicción entre que dice usted que es confuso y que no se sabe que es lo que pido

primero hemos pedido y hemos apoyado al consejero en su rechazo del real decreto

que no le gusta a nadie a unos menos que a otros sino de qué ocurre ahora aquí con ese real decreto

es verdad que no con mis palabras sino con las suyas que se puede

como se venía haciendo hasta ahora es decir y ahora con mis palabras

como si no existiera real decreto con sus palabras es hay informe jurídico que avala

pues muy bien nos gustará ver ese informe jurídico porque

aprobado los protocolos hasta ahora han sido consensuados y aceptados informalmente por eso el real decreto dice que hay que hacer unos protocolos con una serie de componentes que formarán parte de la concepción de dichos protocolos

hasta ahora esos protocolos eran protocolos aceptados informalmente por acuerdo por aceptación de ambas partes para trabajar en equipo

trabajar informalmente y por acuerdo mutuo en equipo ese es el problema

oiga sigan ustedes haciendo con las palabras del señor consejero porque se puede sigan haciendo lo que venían haciendo y lo que le décimos nosotros es diga el informe jurídico que se puede saltar el real decreto que no deben hacer eso y no lo dice la señora roncal lo ha dicho el abogado del estado la realización de todas las funciones que venían haciendo en materia de política farmacéutica

calificado de intrusismo profesional dígame usted que el intrusismo profesional

no sé si lo dirá el informe jurídico del señor consejero estamos ansiosos por verlo tampoco podemos aceptar la rebelión ante el real decreto que propone bildu creemos que las normas todas hay que cumplirlas

trataremos de luchar para derogarlas pero desde luego no nos saltaremos el cumplimiento del real decreto se lo dije el primer día al señor consejero que si los consejeros y se lo digo ahora al lehendakari tuvieran capacidad legal para elegir

sobre qué reales decretos nos gustaría no cumplir respecto a la solución que proponen los médicos hacer un listado de medicamentos en los cuales las enfermeras pueden intervenir

los médicos tendrán criterios muy interesantes pero no tienen competencia legal para hacer

que va a ser aceptado por ambas partes ya sé que lo dicen que es por operatividad pero yo creo que por operatividad no se puede uno saltar las normas

como veníamos haciéndolo pacíficamente por acuerdo y trabajando en equipo pero eso lo ha venido a romper el real decreto así que no existe

y qué es lo que hemos pedido todo el tiempo que esto es responsabilidad del consejero en euskadi

cómo tienen que funcionar las enfermeras en euskadi y que lo diga inmediatamente

que les diga por escrito si es necesario personalmente

que pueden vacunar en las escuelas como venían haciéndolo hasta ahora que puedan hacer la vacunación infantil como la venían haciendo hasta ahora

individualizada médica dígaselo a ellas no hace falta que me lo diga a mí

a las direcciones de enfermería pues las direcciones de enfermería no son todo el colectivo o yo me equivoco

con las direcciones de enfermería o ha hablado con todo el colectivo en fin no por más repetido va a transformar usted señor orbegozo una mentira en verdad

es del consejero el consejero tiene responsabilidad con los ciudadanos en euskadi y con las enfermeras que son las que tienen que realizar determinadas tareas

que jurídicamente pueden hacerlo claro con ese informe jurídico

o decir a los colegios de enfermería que hagan el favor de no intervenir

como ha ocurrido es eso una práctica adecuada y jurídica

dígaselo a las enfermeras que también le están escuchando lo mismo que los médicos a ver si lo que hay que hacer es

no planteamos una rebelión lo que no podemos permitirle es

gracias señora presidenta estoy de acuerdo con la señora roncal cuando afirmaba en su intervención que

estamos hablando aquí de la situación generada y creada tras la aprobación de un real decreto ley con una regulación específica pero yo voy más allá a las

a la nueva normativa en vigor que puede pasar creo que aquí el tema se ha agudizado por la actitud del propio departamento de salud por lo tanto creo que se ha ido más allá

habido y sobre todo se ha generado confusión incertidumbre inestabilidad en un colectivo específico como es el colectivo

de este decreto con las afirmaciones las comunicaciones

como si no hubiera pasado nada y que se obviara la aprobación de un real decreto ley que tiene un contenido

a nosotros desde luego esa actitud nos parece absolutamente incomprensible y sobre todo porque está poniendo

no solo al colectivo de enfermería sino a la propia dinámica de funcionamiento

y del propio proceso asistencial y nosotros en ese sentido pedimos una rectificación por eso pedimos al gobierno vasco que se

en vigor y desde luego que se abstenga como decía de adoptar cualquier medida o efectuar cualquier actuación dirigida a que el colectivo de enfermería de osakidetza lleve a efecto acciones que puedan suponer la vulnerabilidad de la legalidad e incurrir en la comisión de ilícitos

personales yo creo que eso es lo que tiene que salir del debate de hoy si queremos realmente dar un poco de tranquilidad

allá donde se ha generado una situación absolutamente confusa de incertidumbre

su obsesión por hurgar en la herida intentar hacer leña del árbol caído jaurlaritzak betetzen du legea tokatzen zaion bezala

pero el real decreto dice lo que dice y habla y establece un periodo transitorio para aprobar y validar los protocolos y prácticas clínicas

los existentes en virtud de la legalidad vigente no los deroga no lo deroga

no mezcle churras con merinas el consejo general de los colegios de enfermería presentó su recurso y solicitaba también la suspensión del real decreto

de defensor del abogado del estado ni de juez porque no lo soy pero tampoco lo es usted pero sí me he leído su escrito y le recomiendo que vuelva a leer en la página diecisiete habla en todo caso de que si son ciertas las aseveraciones que hace la corporación recurrente sobre la actuación que en ese caso sería un ilícito si son ciertas

en condicional es decir dice que si ha habido prescripción por enfermeros sin cumplir lo previsto en la ley se refiere él más en concreto

eso sería llevar a cabo una actividad de intrusismo

que el consejo general de colegios describe como habitual él mismo lo pone en cuestión pero ya le he dicho yo no soy

su escrito al igual que no lo es usted tampoco pero también afirma

y validarlos y precisamente volvemos a referirnos al periodo transitorio de los cinco años dando a entender que los protocolos en vigor siguen vigentes

a la hora de entrar en vigor el propio real decreto precisamente

viene defendiendo el consejero de salud en todo caso si en esta comunidad autónoma o en cualquier otra se estuvieran cometiendo este tipo de situaciones delictivas como las que usted señala ia hiru hilabete pasa direnean

nosotros seguimos creyendo que hay resortes legales suficientes como para seguir prestando un buen servicio con calidad y seguridad para los y las pacientes y también

para las y los profesionales nosotros creemos que se ha perdido una gran oportunidad para mejorar los servicios sanitarios para poner en valor tanto el trabajo en equipo de profesionales médicos y enfermería y de avanzar en los nuevos roles que este último colectivo debe ir desarrollando kostatzen zaigu sinestea zuk ere horrekin bat egiten

muchas gracias presidenta mi grupo

esta moción consecuencia de la interpelación efectuada

en el pleno de control del pasado cuatro de marzo el impulso para que se iniciara el procedimiento de elaboración y aprobación del primer plan de igualdad de mujeres y hombres en la administración general de la comunidad autónoma vasca se ha realizado gracias al empeño de mi grupo parlamentario los socialistas vascos y lo puse de manifiesto en mi intervención

como antecedente señalar que ya fue aprobada una proposición no de ley presentada por mi grupo parlamentario en la comisión de derechos humanos igualdad y participación ciudadana el veintisiete de octubre de dos mil catorce

por mi grupo parlamentario los socialistas vascos con el grupo nacionalista vasco y los populares vascos y que fue apoyada también por el grupo eh bildu y upyd es decir contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios

en su apartado primero se instaba por el parlamento vasco al gobierno vasco a que agilizara los trámites en el proceso de elaboración y negociación con las secciones sindicales del plan de igualdad de la administración general de la comunidad autónoma del país vasco con el fin de tenerlo finalizado el mismo a la mayor brevedad posible esa mayor brevedad posible fue plasmada

en un calendario de elaboración de dicho plan donde se preveía que se iniciaba ese proceso en enero de dos mil quince y debía de concluir en septiembre

el proceso de elaboración hasta su conclusión definitiva iba a durar casi dos años y para evitar más dilación en el tiempo es por lo que se presenta la moción de hoy y se solicita que el parlamento vasco inste al gobierno vasco

los trámites en el proceso de elaboración y negociación con las secciones sindicales

de la comunidad autónoma vasca con el fin de tener concluido definitivamente ya el plan antes del treinta y uno de septiembre

una fecha de finalización que además la hacemos coincidir con la prevista en el primer calendario elaborado por el propio gobierno vasco no se ha presentado

ninguna enmienda a la totalidad por lo que espero que igual que aprobamos en su día la proposición no de ley por unanimidad hoy aprobemos esta moción en este pleno también por unanimidad en la comparecencia del consejero de administración pública y justicia el cuatro de diciembre de dos mil catorce

que ese plazo nos parecía a nosotros muy largo para la elaboración de dicho plan y ello porque podía ser debido

un número reducido de personas pero al menos lo mínimo que se puede pedir al gobierno es que se cumpla

se marcó no se está haciendo hasta ahora sí que lleva mucho retraso

marcadas en aquel calendario elaborado el cuatro de diciembre del dos mil catorce y acordado en la mesa sectorial en la propuesta presentada inicialmente hace ya más de un año se marcaba en su elaboración cuatro fases una primera fase de comunicación del compromiso de la viceconsejería de función pública para la elaboración del plan de igualdad de mujeres y hombres en la administración general

al servicio de la administración general desde la perspectiva de género donde debía de realizarse la constitución de la comisión técnica paritaria la creación del grupo de trabajo

la determinación de la información que era necesaria y la recogida de esa información

y una vez realizado ese borrador ese diagnóstico debería de ser validado por la comisión técnica para elaborar el primer plan de igualdad y así pasar a una tercera fase la de elaboración del borrador del plan de igualdad

de negociación del mismo la elaboración de este diagnóstico es esencial para poder elaborarlo luego este plan de igualdad y además su elaboración es obligatoria conforme al artículo cuarenta y seis de la ley de veintidós de marzo del dos mil siete sobre la igualdad

estoy de acuerdo en que esta recogida de información como dijo

en el anterior pleno el señor erkoreka lleva tiempo pero el tiempo marcado ya dentro del calendario nos parece nos parecía suficiente

fase de dicho proceso desde función pública se facilitó el dos de marzo dos días antes de la interpelación

el borrador de diagnóstico de situación estamos ahora por tanto en la fase de presentación de alegaciones y validación del texto definitivo en la comisión

esta vez por la consejería de administración pública y justicia sin pasar por la mesa sectorial y presentado junto con el borrador de diagnóstico a los sindicatos

esta fase concluiría mañana según el calendario aprobado en la mesa sectorial y aceptado por el consejero el señor erkoreka inicialmente el diagnóstico previo debía haberse concluido ya para septiembre

empezado a avanzar en el cuarto trimestre del dos mil quince y concluido antes de finalizar marzo

inicial ustedes han vuelto a reactivar su elaboración gracias a la interpelación presentada el pasado cuatro de marzo por mi grupo parlamentario tómenselo

en serio pues su elaboración tiene una gran importancia

una asignatura pendiente para la administración general en nuestra comunidad autónoma cuando se supone que precisamente esta administración es la que debería dar ejemplo a los demás pero ahora quieren hacer en dos meses

en nueve meses tengo mis dudas de que el resultado pueda ser el mismo hablemos ahora de la tercera fase del proceso una vez concluido la elaboración y el diagnóstico previo la fase de elaboración del primer plan de igualdad y su fase

nueve meses en este plan se tienen que proponer acciones evaluables que permitan comprobar si se alcanza el objetivo de igualdad inicial y tiene que tener una vocación de permanencia en el tiempo en esta fase se tiene que elaborar el borrador del plan de igualdad

del mismo en qué consiste esa fase de contraste se ha de remitir dicho borrador del plan en fase de contraste a la comisión interdepartamental para la

al grupo técnico interdepartamental a las unidades de igualdad de cada departamento así como a toda la plantilla para que formulen las observaciones y consideraciones que estimen pertinentes si ustedes quieren remitir según su nuevo calendario facilitado el dos de marzo de este año el primer borrador del plan de igualdad

quieren aprobar el borrador en una comisión técnica y realizar toda la fase de contraste del veinticinco

me quieren explicar cómo van a pedir el contraste a la comisión al grupo interdepartamental

en tan solo cuatro días es imposible cuanto menos

suena un poco a pitorreo desde luego nos encomendaremos a san prudencio

pues a lo mejor así lo tenemos esta fase estaba prevista

que duraría tres meses intenten acordar estos plazos pero acortarlos pero tanto como reducirlos de tres meses a cuatro días no salvo que lo que quieran es dar una apariencia de que van a contrastar algo pero que realmente no van a contrastar nada

aprobar el borrador elaborado tal cual lo hayan realizado ustedes seamos serios actuemos de una vez correctamente

de la participación de los trabajadores una quimera

cada cosa que viene plasman que no hay una verdadera negociación para nada elaboremos y contrastemos el plan como dios manda con la participación real y efectiva de aquellos que han de intervenir y contar con las opiniones que se aporten desde ahora a septiembre hay tiempo

de la comunidad autónoma vasca y negocien de una forma real y efectiva

y no me sirve de escusa como señaló en el pleno del cuatro de marzo el señor erkoreka

sesiones formativas para justificar el retraso sufrido porque esa era una obligación que debía de cumplirse que ya venía recogida

en octubre del dos mil catorce el veintisiete de octubre pero que

y cumplir el calendario marcado desde el principio ustedes

con suerte cuatro años es decir todo una legislatura a nosotros nos parece lamentable demuestren de una vez que el gobierno vasco tiene un verdadero compromiso con la igualdad de mujeres

una de las cuestiones que se tratan dentro de los planes de igualdad

de conciliación de la vida laboral y familiar apuesten por una elaboración del plan de igualdad en la administración general de la comunidad autónoma vasca pero solo será una fachada si no va acompañado de una búsqueda y una apuesta real por la conciliación de la vida laboral y familiar en la actualidad

ahora mismo tal cual nos trasladan ellos a nosotros medidas de conciliación que empeoran las que tenían hasta ahora según manifestaciones de los mismos

por la igualdad yo creo que no por todo ello le pido a todos los grupos

a la iniciativa que hoy presentamos aquí nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea

sí muchas gracias presidenta en el capítulo tercero de la ley tres barra dos mil siete para la igualdad efectiva de

y más concretamente en su artículo cuarenta y cinco se recoge el carácter obligatorio de la elaboración de los planes de igualdad en aquellas empresas con más de doscientos cincuenta trabajadores

de que estos planes sean negociados del mismo modo queda claramente recogido en la disposición adicional octava de la ley siete barra dos mil siete del estatuto básico del empleado público las administraciones públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y con esta finalidad deberán adoptar cualquier tipo de discriminación laboral

sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior las administraciones públicas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo u acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable en los términos previstos en el mismo

de nueve de marzo por el que se aprueba el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario al servicio de la administración de la comunidad autónoma de euskadi

elaboración se dice de un plan de igualdad en el ámbito de la administración general de la comunidad autónoma del país vasco en los términos establecidos en el artículo cuarenta y seis de la ley de igualdad durante el periodo de vigencia del acuerdo se realizará una labor de diagnóstico análisis y fijación de objetivos estrategias prácticas y el establecimiento

y evaluación es decir queda patente como se ha explicado perfectamente la obligación legal de aprobar un plan de igualdad negociado para la administración pública vasca esto es por tanto obvio y no cabe ninguna duda el problema está como siempre en la demora en ejecutar por parte de este gobierno temas que parece

por cierto este gobierno y el gobierno anterior aunque sí se han dado pasos adelante no se han dado los suficientes o no al menos al ritmo deseable y necesario para cumplir los plazos establecidos con un nivel de calidad suficiente por un lado tenemos al consejero que afirma que los trabajos se han ralentizado para mejorar la calidad

a propuesta suya echando de alguna forma balones fuera por otro se encuentra la argumentación de la proponente que deja patente su preocupación ya que no es solo que después de quince meses todavía no se haya concluido la segunda fase del proceso

de elaboración del diagnóstico o haya sido muy recientemente finalizado

se presenta un plan de trabajo efectivamente como se ha explicado realizar en dos meses lo que en un principio se había planificado

en nueve meses esta cuestión es la que más nos preocupa consideramos este plan una prioridad porque desde upyd no pretendemos que este plan como tantos otros se quedé en papel mojado si no que efectivamente incluya medidas cuanto antes que sean efectivas para la igualdad de mujeres

perfectamente estudiado argumentado y

tengamos el mejor plan posible estos planes no son simplemente

puede significar modificaciones sustanciales de la vida de los trabajadores y trabajadoras

y familiar y por supuesto a la igualdad misma entre mujeres

importantes es cierto que un informe diagnóstico de calidad es imprescindible para la realización de un buen plan del mismo modo que el proceso de negociación facilita el diseño

la demora en la elaboración del plan de igualdad por esta razón apoyamos la iniciativa presentada por el grupo socialista para agilizar la elaboración

a la calidad del mismo este plan tendría que haberse aprobado hace tiempo todavía no lo tenemos se trata de que cuanto antes

vigente posiblemente corresponda a varios gobiernos en fin nosotros lo que esperamos es que este plan pueda aprobarse cuanto antes

presentó la excusa perfecta basándose en que los plazos se han dilatado por iniciativa de la comisión técnica

del plan y que este sea de mayor calidad bueno puede ser una excusa utilizada en un momento determinado pero creo que no puede ser una razón suficiente

de este plan de igualdad creo que todos compartimos la misma idea creo que todos compartimos los mismos propósitos no se han presentado enmiendas y por lo tanto me imagino que esta iniciativa

por unanimidad es una moción correcta salvo en el error que contiene septiembre no tiene treinta y uno días si no que tiene treinta esa era la única razón que nos hizo pensar en la posibilidad de presentar

no lo hicimos y aprobamos la iniciativa socialista gracias eskerrik asko

mi grupo lógicamente va a apoyar la moción

usted razón y hace bien en emplazar de nuevo a este parlamento instarle

a que salga adelante este plan de igualdad puesto que el tiempo apremia los plazos avanzan la legislatura llega a su fin y a día de hoy todavía no contamos con él

apoyamos la proposición no de ley creo que fue una de mis primeras votaciones como parlamentaria cuando llegué a esta cámara y en sentido estricto como afirmaba la semana pasada el señor erkoreka no se ha incumplido la proposición no de ley

lo único la interpretación porque el primer punto hablaba

no se concretaba a qué se le llama brevedad es evidente que no tenemos todos el mismo concepto del tiempo

había que en futuros presupuestos destinar partidas presupuestarias para ejecutarlo eso me temo que no va a haber ocasión

ni se incumple ni se deja de incumplir y por último el tema de la formación que sí

incumplido pero aún así aunque no hubiera existido esa proposición no de ley y aunque no existiera esta moción que va a salir hoy adelante el caso es que el gobierno vasco y el consejero tiene la obligación legal de

la señora sánchez y el señor maneiro ya se han dedicado a recordarnos de nuevo cuál es todo el marco jurídico que le da obligatoriedad a esa encomienda y casi nos ha parecido usted

con los plazos lo que ocurre es que no tenía ánimo de enmendar su moción pero

para esa fecha es harto probable que este parlamento esté disuelto pues es una pena que no vayamos a tener ocasión de conocer el plan incluso

se cumple con la moción que hoy aprobamos desde luego más allá de aprobar la moción que usted nos presenta a nosotros no nos cabe otra que esperar a que se presente el plan a esta

el consejero compareció en la comisión además que fue muy profuso en explicaciones de toda índole

desde el preámbulo jurídico para conocer hasta la intrahistoria de cómo se llevó adelante las leyes de igualdad hasta todo el cronograma la impresión que una se llevó después de la comparecencia sí o sí y con eso me quedé en esa comparecencia yo creo que fue la impresión que transmitió a todos los parlamentarios y parlamentarias

respuesta a su interpelación a la interpelación que le formula la señora sánchez lo que creo es que bueno que casi se estaba ya justificando y

no ha cubierto las expectativas que creó en esa comisión

socialista que es quien ha tenido las iniciativas en esta materia y además

el gobierno vasco y usted mismo se pone las pilas a golpe de iniciativa parlamentaria y alguna que otra razón por lo menos sí parece que le esté dando para que lo piense

que se han extendido para explicarnos todo el procedimiento

todo el funcionamiento todas las fases y a pesar de ello aquí

que volver a aprobarla el caso insisto es que el tiempo

iniciativa parlamentaria por parte del grupo socialista y que aunque no le quedaba más remedio que hacer el plan sí o sí

que es importante que lo traiga a esta cámara cuanto antes

y que podamos contar con él porque es una herramienta importante y porque yo creo que una legislatura
es más que tiempo suficiente para poderlo elaborar y para poderlo aprobar gracias eskerrik asko ruiz andrea

este plan de igualdad como bien se ha dicho aquí por las personas que me han antecedido en el uso de la palabra tenía que estar aprobado tenía que estar aprobado ya desde dos mil siete cuando el gobierno vasco firmó un acuerdo regulador

en dos mil diez cuando se adquieren los compromisos laborales derivados de los acuerdos de las condiciones de trabajo y los convenios colectivos del personal laboral de la administración general de araba bizkaia y gipuzkoa claro qué décimos con esto que dos formaciones políticas diferentes partido nacionalista vasco y partido socialista que han tenido responsabilidades no han cumplido con esta obligación con este mandato legislativo pero no solo eso sino que además la propia ley de igualdad como ya se ha dicho aquí establece la obligatoriedad de llevar acabo este plan en el artículo cuarenta claro

pero es necesario y es ahí donde nos tenemos que centrar la segunda fase de la elaboración del mismo

la parte más importante para este grupo que es el diagnóstico esa radiografía que se tiene que hacer de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de las administración general de araba bizkaia y gipuzkoa

de diagnóstico elaborado si no estoy mal ciento cuarenta y cinco folios tengo de hecho mucha curiosidad por conocer este informe porque ya

evaluaciones de impacto de género de los presupuestos del gobierno vasco traen datos de la administración general de araba bizkaia y gipuzkoa y nos dan datos cifras demoledoras claro estamos hablando que

que el setenta por ciento son mujeres pero además que los rangos inferiores en los de menor rango en el ochenta y uno por ciento de los casos los desempeñan las mujeres los dos rangos más altos estamos hablando que un setenta por ciento de los casos son desempeñados

mujeres claro estamos hablando que la brecha salarial sigue siendo del treinta por ciento estos son cifras oficiales que se adjuntan a los presupuestos además no olvidemos que las trabajadoras de la administración son las más precarizadas y también las que más recortes han sufrido sanidad los servicios fundamentales que tenemos que tener garantizados y de máxima calidad y son las que han tenido un mayor número de situaciones de recorte y de precariedad claro esto

nos planteaba en la comisión cuando estuvo que hacía referencia por una parte

que es real de la precariedad en la administración pública

a cuestiones muy importantes y es la necesidad de negociar

la necesidad de negociar este plan porque lo manifiestan en ocasiones anteriores con planes como el de lanbide por ejemplo

y así tienen el plan que tienen que no se desarrolla no se lleva a cabo y no hay ningún tipo de identidad con dicho plan

a las múltiples deficiencias que plantea la propia administración un elemento fundamental es

claro qué pasa que nos hacía referencia a una situación personal esta representante sindical en torno a esta cuestión estamos hablando de representante sindical para el plan de igualdad de la administración general

formación fundamental continua que ella por ejemplo como técnica de lanbide y tutora en este caso de violencia machista

no tenía ningún tipo de formación al respecto solamente había un protocolo colgado en la intranet que según sus propias palabras era farragoso y obsoleto es decir ningún tipo de tratamiento especial como así o

como la propia ley de igualdad de la formación continua a las trabajadoras y trabajadores de la administración

cuando se plantea esta propuesta hablamos de la contratación pública y en este sentido

manifestar que se ha rechazado por esta cámara una iniciativa legislativa

precisamente a las cláusulas sociales en la contratación pública una propuesta que contenía un apartado muy importante una propuesta que añadíamos como enmienda nosotras y es precisamente las condiciones

que como bien hemos dicho son absolutamente lamentables y están en situación de verdadera precariedad claro la señora sánchez también nos hacía referencia a la conciliación y efectivamente compartimos esa necesidad pero claro

para un proyecto piloto en un departamento de la administración pública para llevarlo a cabo para un permiso de paternidad y o maternidad iguales

precisamente en la conciliación y por tanto en corresponsabilidad no se aprueban y desde luego efectivamente

llevándose a cabo o no llevándose a cabo claro hablamos de planes de igualdad son fundamentales los planes de igualdad pero los planes de igualdad no nos garantizan

completamente igualitaria muchísimos planes de igualdad y lo sabemos están en un cajón

para que la empresa privada o pública pueda legitimar y pueda

que avanza en términos de igualdad pero si no se desarrollan si no se ponen medios materiales y medios económicos y humanos desde luego

poco se va a hacer y esto en qué se basa en la voluntad política en este sentido sí le décimos señor erkoreka

cristina uriarte porque al fin y al cabo es departamento de toda la administración

les solicito el compromiso porque este plan no me cabe duda de que se va a elaborar pero tiene que haber

centrales sindicales y es que sea negociado que sea un plan que se identifique con el conjunto de las organizaciones sindicales

en cada departamento del gobierno vasco cumplimiento cumplimiento es lo único que pedimos hemos tenido la batalla hasta ahora durante este tiempo

se elaborara este plan para que se llevara a cabo y además ahora vamos a aprobar una propuesta

no nos importa tanto el tiempo como que cuando este plan venga verdaderamente cuente con el respaldo de este gobierno y se lleve a cabo se ejecute porque

es el sector más precarizado y el sector al que más énfasis tenemos que poner eskerrik asko

no podemos olvidar que es un derecho fundamental con el que nacemos pero a medida que

la igualdad no es un privilegio es un derecho que en la teoría existe

afortunadamente este gobierno ha trabajado trabaja y seguirá trabajando para que el objetivo que hoy nos ocupa algún día sea una total realidad

no es necesaria porque las explicaciones que más de una y dos veces se han dado y concretas por un lado nos roban tiempo para poder tratar otros temas que seguramente no estén tan avanzados y estudiados como este pero por otro lado y por verle

cómo está este plan de igualdad de volver a explicar cómo está el diagnóstico fase esencial y sumamente necesaria e imprescindible para poder elaborar el plan

el porqué de esta moción volvemos a explicar los pormenores de este proceso una vez más resulta necesario aclarar

se alarga no es porque no se haya trabajado y no se trabaje o se haya trabajado y se trabaje a un ritmo muy lento nada más lejos de la realidad

con mucha información información que hay que estudiar que hay que analizar exhaustivamente sacar conclusiones ver realidades ver necesidades detectar carencias y problemas y cuando toda esa información que como he dicho es mucha ha sido analizada detalladamente se trabaja para elaborar el mejor

para la administración general posible un plan real práctico consensuado valorado y lo más importante aplicable y eficaz un plan real y realizable toda esta información enriquece el diagnóstico y el posterior plan

necesite más tiempo para que nada escape y contar con un buen documento

del ámbito de la administración general y sus organismos autónomos se establece una comisión técnica con carácter de órgano colegiado paritario en la que hay representación de la administración y representación sindical la comisión técnica es la encargada de validar

del primer plan está realizando el grupo de trabajo este grupo cuenta con el asesoramiento técnico de la unidad administrativa de igualdad del departamento

es informado mediante intranet y también mediante correo electrónico la comisión técnica ha mantenido las siguientes reuniones se constituye el diecisiete de febrero del dos mil quince el veinticuatro de febrero se aprueba el reglamento y se da paso a acciones de comunicación

dirigido a toda la plantilla se colocan carteles informativos en los centros de trabajo el tres de marzo comienza el encargo al grupo de trabajo de los datos necesarios para la elaboración del diagnóstico el veintisiete de marzo se acuerda los indicadores previstos para la obtención de información se sigue trabajando

y emakunde ofrece a la comisión y al grupo de trabajo un programa formativo dirigido a facilitar la elaboración de un diagnóstico y un posterior plan

y segundo dotar de herramientas para la elaboración e interpretación del diagnóstico y plan de igualdad

no olvidemos que el primer paso es contar con un buen y completo diagnóstico para posteriormente saber interpretarlo y poder plasmarlo para redactar un plan práctico y eficaz el once de marzo del presente año se presenta en la comisión técnica el borrador del diagnóstico

y perfilarlo siguiendo las aportaciones y sugerencias de la misma comisión

es el siguiente el once de marzo se realiza la reunión de la comisión técnica de igualdad para el análisis y las aclaraciones del primer borrador

mañana se remitirá por correo electrónico a la comisión técnica de igualdad el segundo borrador con las modificaciones que se estimen oportunas se remitirán también las medidas

el quince de abril se procederá a la remisión del primer borrador del plan el veintidós del mismo mes se reunirá la comisión técnica para aprobar el borrador del primer plan

contraste interno y final del borrador dentro del grupo de trabajo

para enviarlo a la mesa de negociación alguna de estas fechas puede variar por la festividad de san prudencio y durante el mes de mayor

dicho plan por lo tanto teniendo en cuenta todo lo que aquí se ha dicho bastante claro que se ha trabajado y se sigue trabajando irailaren hogeita hamaika baino lehenago egongo da plana

y a la elaboración de este plan de igualdad exactamente igual que usted la verdad

y lo hemos puesto todos los grupos parlamentarios encima de la mesa ustedes son los únicos que nos están haciendo perder el tiempo a los demás

se plantearon en un primer momento han perdido siete meses lo he dicho claramente en mi primera intervención quién es el que pierde el tiempo aquí

con las obligaciones que asumen y como en la enmienda transaccional que aprobamos el veintisiete de octubre todavía en aquel momento no estaba elaborado el calendario y dentro del calendario que se elaboró a posteriori el cuatro

ya se pusieron unos plazo y ustedes se van saltando todos los plazos

volver a traer este tema aquí con esta moción

porque sino ustedes se toman lo de a la mayor brevedad posible

entonces como el calendario era posterior a aquella proposición no de ley

hacerlo coincidir con la fecha que ustedes mismos pusieron que era finales de septiembre de acuerdo que ha habido un error que se ha saltado de un cero a un uno el treinta de septiembre me da igual pero que cumplan ustedes con el plazo que han marcado

aquí y que además lo hagan de una forma correcta es decir hagan la fase de contraste

ustedes este primer plan lo llevaron a la mesa sectorial pero este segundo que ustedes presentaron el dos de marzo ustedes lo han hecho de forma unilateral sin ir a la mesa sectorial y eso es un hecho y ustedes lo acompañaron

con el borrador del diagnóstico que acababan de finalizar eso también es otra realidad y encima han hecho una velocidad aquí increíble que lo he explicado mucho más clara yo en mi primera intervención y no me voy a extender pero es

me quieran hacer toda la fase de contraste teniendo que preguntar en cuatro días hasta a toda la plantilla a todas las unidades de igualdad etcétera etcétera a todos los que ya he dicho antes que había que preguntar en esa fase

hagamos las cosas bien ustedes han hecho un deprisa y corriendo porque tenían que

y han hecho aquí una reducción que es un poco irrisoria háganlo bien negócienlo bien y hagan la fase de contraste bien para que el primer plan de igualdad de la administración general de la comunidad autónoma vasca sea un buen plan no sea una porquería hecha deprisa y corriendo y sobre todo

del diagnóstico rapidito venga las alegaciones en dos segundos el plan hago el borrador y venga los contrastes en cuatro días

vamos a hacerlo de una forma seria y hagamos una verdadera participación real y efectiva con los trabajadores y con la representación de los trabajadores

es que tenemos tiempo hasta septiembre y yo no he querido recortar ese plazo porque he querido hacerlo coincidir al menos con el que ustedes dijeron bueno y de todas formas señora ruíz

no sé cuando se convocaran las elecciones eso le corresponde a este gobierno pero aunque se convocaran las elecciones

los gobiernos siguen en funciones y pueden seguir trabajando entonces pues de aquí a septiembre

y con la comisión técnica para seguir trabajando y elaborar el plan de igualdad y tenerlo concluido antes de que finalice septiembre pero por favor háganlo bien

de la administración general de la comunidad autónoma vasca y va a servir de modelo para los demás ustedes son la administración general el gobierno vasco y van a seguir de modelo a otras administraciones

eskerrik asko señora sánchez se queja por todo

se queja le vuelvo a decir que la fase del diagnóstico es fundamental la información obtenida es amplia por lo tanto el ritmo de trabajo se adecua a esa cantidad de información

es un plan consensuado por unanimidad un proceso consensuado

con todos y cada uno de sus ámbitos competenciales el compromiso de establecer y desarrollar políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades de mujeres en la administración general de la comunidad autónoma así como su compromiso de impulsar y fomentar la implantación de las medidas necesarias para conseguir

en el seno de la organización trabaja y trabajará con el objetivo de convertir la igualdad en un principio estratégico de su política corporativa y de recursos

y medidas que se han adoptado y adoptarán durante este proceso

entre la administración y la representación sindical

de todas las reuniones de la comisión técnica que cuentan con actas pero también ha habido numerosas reuniones del grupo de trabajo grupos de trabajo formados por distintas personas según el tema que se fuese a tratar estas reuniones

por lo tanto el ritmo de trabajo ha sido constante sin interrupciones un ritmo de trabajo adecuado a la carga de trabajo valga la redundancia

la unanimidad en las decisiones y acuerdos alcanzados una constante los sindicatos están de acuerdo unanimidad en el proceso y en los resultados el diagnóstico es completo y cuenta con mucha información

vamos a votar a favor de esta moción que no tiene para nosotros razón de ser porque este proceso de elaboración del plan de igualdad ha tenido un ritmo de trabajo

le consta no porque su planteamiento tenga razón es nuestro voto a favor sino porque los plazos se van a cumplir y desde luego